la verdad es que no se comprende la externalización de la tarea legislativa que de precarizar la función pública favorece es inevitable favorece la influencia de empresas privadas y en este caso por ejemplo si pensamos en el ámbito que nos ocupa hoy pues empresas tales como

o grupo mondragon son empresas sabemos que funcionan como puertas giratorias que influyen en el contenido de las leyes y que además ahora incluso igual es que se les estaría hasta pagando por escribir las leyes hoy precisamente hemos conocido una sentencia por la cual se condena al pago del seis coma tres millónes de euros a consultoras

por crear redes de captación de contratos públicos y entre estas consultoras está por ejemplo pricewaterhouse que fue la consultora que hizo el primero de los listados

en euskadi por lo tanto la cautela la cautela tiene sentido legeak egiteagatik

iberdrola petronor edo mondragon taldeari hain zuzen ere en todo caso la cuestión hoy es incidir tener subrayar cuáles son las nuevas propuestas del gobierno vasco en clave energética

de armentia o la fallida aventura de los pozos de gas las nuevas propuestas que

el gobierno vasco no sé si el partido socialista también

por una parte apostar por las centrales eólicas entre paréntesis o añadido diría en espacios protegidos y de la mano de iberdrola dos las megaplantas

de la mano del grupo mondragon y el pelotazo del hidrógeno de la mano de

mediante el hidrógeno producido mediante gas empecemos

actualmente conocemos que hay seis proyectos de centrales eólicas

en contra de las primeras tres centrales eólicas que han entrado en la fase de alegaciones que son las de los montes de iturrieta sierra de arkamo y labraza todas ellas están participadas por aixeindar es decir

e iberdrola tanto elkarrekin podemos

hemos alegado porque hemos entendido entendemos que estas centrales provocan graves impactos en los espacios naturales protegidos y en la vida de los pueblos pero también

a toda velocidad sin planificación porque aún no se ha aprobado el plan territorial sectorial de energías renovables y

fue suspendido en dos mil nueve por este parlamento es decir que no hay un plan realmente vigente para regular estas instalaciones

la ley de cambio climático obliga lo dijimos también la vez anterior a que las centrales eólicas y fotovoltaicas también

queden fuera de zonas ambientalmente protegidas sabemos ahora que varias de estas centrales eólicas

proyectadas por el gobierno vasco e iberdrola se ubican dentro de estas zonas de exclusión

decimos la ley afecta tanto a las centrales eólicas como a las

en araba y no sabemos ciertamente realmente si están todas ellas dentro o fuera de zonas de exclusión

y si no lo tiene claro por qué se sigue adelante con estos proyectos la ley advierte además de qué planes o estrategias en torno a las energías renovables se deben realizar fomentando la participación pública mediante dice

los pueblos que están afectados que se han organizado como arabako mendiak que

en contra de estos proyectos han sido escuchados en algún sitio

han tenido hueco en algún proceso participativo a partir de la aprobación de esta ley de cambio climático y sin el plan territorial sectorial de energías renovables aprobados la cuestión es se van a seguir tramitando estas megaplantas eólicas y solares

a toda velocidad o nos paramos un poquito e intentamos ajustarnos a lo que dice la ley por todo esto

instamos al gobierno vasco a establecer una moratoria temporal a la tramitación y a la autorización de las centrales

y fotovoltaicas de euskadi para poder adaptarlas debidamente a la ley de cambio climático y transición energética que hoy se aprueba y a la que sea la futura aprobación del plan territorial sectorial de energías renovables en euskadi

es verdad que en nuestra moción instábamos también a esperar a la aprobación de la ley pero sabemos que hoy por fin se aprobará la ley

a la ley ya aprobada y también además

en nuestra moción instábamos a que el futuro plan territorial sectorial de energías renovables integre

y el medio ambiente y que además vuelvo a repetir lo que estaba diciendo antes se garantice la participación ciudadana

en su vida diaria es verdad el grupo

nos han propuesto una enmienda en la que se insta a que el plan territorial se realice con el mayor consenso político y social posible y eso está bien sí pero claro la cuestión es en qué se materializa esto porque en el decreto

ya se habilita un programa de participación pública en el procedimiento para aprobar los planes pero sin embargo si nos fijamos en el fondo de este proceso

lo cierto es que en el fondo se limita a facilitar información en un primer momento información y después recabar alegaciones pero

se les hace ningún caso y no se introducen en un procedimiento

más interactivo claro si no se

participativos cómo se puede esperar que existan consensos amplios no es

creemos en todo caso que es fundamental es muy importante que no se aplique el rodillo es importante creemos que se haga un pacto de país respecto al modelo energético

este parlamento aquí que no se vaya en contra de la ciudadanía una ciudadanía y unos partidos políticos también que en su día dijeron que no al fracking que no a los pozos de gas de armentia y que ahora

no a las centrales eólicas y a las megaplantas solares que destruyen la naturaleza y la vida de los pueblos lo cierto es que incluso instamos a que cumplan su propia estrategia energética vasca dos mil treinta

recoge recomendaciones de medidas ambientales e implican

producción local de energía y de manera descentralizada las centrales eólicas y las

no son proyectos cercanos a los lugares de consumo ni están descentralizados están en zonas rurales lejanas a los lugares de consumo y la generación se centraliza en manos de muy pocas empresas en la enmienda que nos proponen el grupo nacionalista y el grupo socialista también

se insta se introduce una enmienda instando a que los proyectos

los criterios de la estrategia vasca de euskadi pero no dice nada

que es donde se especifica un poquito más para qué

no se va a adaptar la estrategia vasca a las exigencias de la ley de cambio climático

de hecho en la enmienda en una de las enmiendas también y es sorprendente se nos pide que apoyemos

y hoy la deberíamos apoyar sin tiempo para analizarla siquiera no queda muy bien suena tiene pinta se ve como rodillo como prisa una vez más

en estos cuatro años que parece que puede resultar más fácil que en otras ocasiones

azken batean y es también curioso y llama la atención que

que es lo que creemos que se genera se disimule un poco

ekiola es una sociedad creada por el gobierno vasco

una vez más con el grupo mondragon para fomentar el autoconsumo pero la cuestión es qué modelo de autoconsumo ekiola

y en esta última destaca la participación de repsol generación eléctrica

y cuál es su intención su papel en este nuevo negocio porque claro sí podría pensarse que con ekiola lo que se hace es ayudar

energéticas ciudadanas y que el objetivo es que aquellos clientes que dejan de pagar la factura de electricidad

empiecen a pagar la factura a repsol y al grupo mondragon por la gestión mantenimiento y comercialización de la energía generada no lo sé

que queda en el aire por terminar de desgranar este modelo energético

hacer referencia al corredor de hidrógeno al que ya hice referencia

en aquella ocasión con referencia a esto en la enmienda que nos presentan también el grupo socialista y el grupo nacionalista

se quiere decir que los fondos vayan a proyectos de hidrógeno verde proveniente de energías renovables pero claro en este contexto que estamos explicando lo que esto significa es que les demos fondos gratis a petronor e iberdrola para que instalen centrales eólicas

a nuestra costa para producir hidrógeno y usarlo como materia prima para producir combustibles sintéticos y fertilizantes

es darles dinero para que hagan negocio y

bat esan zenuen euskadi es una comunidad de referencia en la lucha contra el cambio climático

que no que no es una comunidad de referencia en la lucha contra el cambio climático y ahora voy a dar algunos datos eta bestea izan zen

primer error siempre ponemos como referencia el año dos mil cinco en vez de poner el año mil novecientos noventa como se ha puesto

o como se hacen todas las planificaciones de todos los países europeos incluida la unión europea para qué para que parezca que desde el dos mil cinco hemos reducido un veintisiete por ciento

emitíamos veinte millónes de toneladas de ce o dos en el año mil novecientos noventa hoy emitimos casi diecinueve millónes de toneladas hemos bajado una y pico toneladas en treinta años en los próximos treinta

el resto de las diecinueve el resto de las diecinueve nik uste dut hori esan behar dela eta hori aitortu behar dela eta klima estrategiak

ere ez la estrategia energética que está en vigor hoy nos está hablando de un veintiuno por ciento de consumo renovable

está hablando de un cuarenta y dos por ciento con lo cual tenemos un problema

aldaketa klimatiko eta trantsizio energetikorako lege bat hace tres legislaturas que se anunció que se iba a aprobar una ley climática la legislatura de lópez se

no se presentó en la siguiente la anterior a última hora

está hablando de una reducción de gases de efecto invernadero de cincuenta y cinco por ciento con respecto a mil novecientos noventa

una política climática nueva para adelantar al dos mil cuarenta y cinco esa neutralidad en carbono la neutralidad del carbono es una cosa la verdad es que yo no sé cómo vamos a andar para

desde luego muy complicado pero supone para que se hagan una idea reducir a cero lo que es hoy día la mayor producción de este país pero si nos preguntaran qué produce este país mayoritariamente pues todos podemos pensar yo qué

áridos para construcción no la mayor producción de este país es ce o dos

o sea que tenemos que pasar la mayor producción de este país

y para eso tenemos que hacer una transición energética

miren nosotros defendemos las energías renovables y creemos que es de vital importancia su implantación

eso también y lo que también es importante es el mantenimiento y el cuidado de la biodiversidad

y la moción que presenta elkarrekin podemos viene a redundar en la pnl que presentamos hace unos meses el partido popular ciudadanos para que no se instalara ningún tipo de parque eólico hasta que no se realizara un nuevo pts de renovables en euskadi

no era para distraer o retrasar la implantación de los parques eólicos sino para lo que queríamos era actualizar el pts

que no existían en el año dos mil dos y que ahora sí existen y si los emplazamientos antes eran los únicos ahora pueden existir más opciones o no

en el año dos mil nueve esta cámara llegó a un acuerdo en dejar de lado el pts del dos mil dos que era tan contestado

por los ayuntamientos por las diputaciones y por los ciudadanos

con un amplio consenso social pero qué pasa doce años sin pts quince años sin la implantación de parques eólicos

a cuando uno no hace los deberes llega el periodo de exámenes y nos entran las prisas y queremos implantar todas las energías renovables para llegar a los estándares que nos estamos poniendo a nosotros mismos

que era de vital importancia colocar o sea crear un nuevo o redactar un nuevo plan territorial sectorial de energías renovables con el amplio consenso que necesita para que así no se tirara por el camino de crear

y en el camino perdiéramos montes de vitoria

biodiversidad importante zonas protegidas en ningún momento tenemos que dejar atrás con la excusa de producción de energía renovable es que esto tiene que ir acompañado la lucha contra el cambio climático tiene que tener un equilibrio un equilibrio de mantenimiento de la biodiversidad de mantenimiento paisajístico

que no generen más ce o dos al medio ambiente entonces claro a consecuencia de aquella proposición no de ley que nosotros presentamos hace unos meses pues ahora resulta que el otro día el cuatro de mayo la consejera tapia dice que bueno que se están realizando estudios de viabilidad para ubicar

y vamos a ver vamos a ver esto tendría que hacerlo

en gipuzkoa en bizkaia y en álava recogidos en un nuevo plan territorial sectorial

llevar a cabo hoy en día en el año dos mil dos las turbinas de los molinos de viento

tan buenas o tan que no tenían una tecnología tan avanzada como la que tienen ahora entonces nosotros lo que hacemos y con nuestra enmienda de adición lo que queremos decir es

la posibilidad de modificar o de actualizar las turbinas de los parques de los molinos de viento que tenemos hoy en día ya instaladas en euskadi para que aumente la producción de energía de sus parques que ya tenemos

renovables tenemos a día de hoy con la tecnología a día de hoy y luego ya veremos dónde tenemos que instalar nuevos parques eólicos sucede lo mismo con las

energía solar vale tenemos que producir energía solar tenemos que recaudar energía de las placas solares pero vamos a ver

que nos diga dónde viene mejor esa ubicación vamos a seguir estropeando la biodiversidad

y las zonas protegidas de euskadi no todo eso tiene que ir acompañado y acompasado y tiene que adaptarse un plan de hace veinte años

y entonces lo que vengo a reprochar en realidad es que no se han hecho los deberes y ahora de repente nos entra la prisa y queremos hacer todo rápido y corriendo y creo

de calma teniendo las cosas bien pensadas y sin hacer todo rápido corriendo con

los informes que sean los que tengan que autorizar la implantación de esos parques porque somos nosotros los que tenemos que cuidar la biodiversidad aquí y el paisaje aquí

a este pleno un tema que se puede considerar ya casi como clásico

encima es un tema a mí me apasiona porque es tan general es tan amplio

como dice el chiste aquí cada uno baja y habla de su libro menos yo que voy a hablar del mío

centrar un poco el tiro en la perspectiva que yo tengo porque al final creo que estamos cada uno dando un tiro a un mosquito diferente y a cañonazos además

porque hoy en este mismo momento se está debatiendo en el congreso de los diputados la aprobación definitiva de la ley de cambio climático y transición energética hoy por tanto muchos de los grupos que estamos aquí representados impulsaremos con nuestro voto a favor una ley que ha venido para quedarse

que ya es una realidad hoy damos un paso de gigante un salto adelante hacia el nuevo mundo que queremos dejar a las generaciones venideras hoy

con el partido nacionalista vasco con euskal herria bildu en el congreso de los diputados para firmar

y respetuoso con el medio ambiente una ley fruto del firme compromiso socialista que como diría el presidente pedro sánchez bien vale una legislatura

en este mismo estrado en esta misma cámara ya lo hacía en la anterior legislatura mi compañera natalia rojo y así lo he seguido haciendo yo en esta misma legislatura mil veces

era el marco sobre el que íbamos a pivotar todas nuestras acciones un marco institucional necesario para orientar y coordinar con éxito el proceso de recuperación

duradero y neutro en carbono una ley que establece un marco de credibilidad frente a la ciudadanía

e internacionales una ley encaminada a dotarnos de un sistema energético propio del siglo veintiuno

descentralizado y digitalizado que garantice que antes de que alcancemos la mitad del siglo nuestro sistema eléctrico sea cien por ciento renovable

que avanza hacia una economía descarbonizada y segura lo que implica un uso responsable y coherente de los recursos no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración permiso de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos

el cese de la producción de carbón se propone un nuevo calendario para la desinversión en productos energéticos de origen fósil se fomentan los gases renovables se establecen objetivos anuales de integración de energías renovables

se establecen también unos mínimos inquebrantables de ambición que serán revisables única y exclusivamente siempre al alza las emisiones del conjunto de la economía española en el año dos mil treinta deberán reducirse como mínimo un veintitrés por ciento respecto al año mil novecientos noventa

antes del dos mil cincuenta en el año dos mil treinta deberá alcanzarse una penetración de energía de origen renovable en el consumo de energía final de al menos un cuarenta y dos por ciento un sistema eléctrico con al menos un setenta y cuatro por ciento de generación a partir de energías de origen renovables los socialistas mantenemos una postura

de coherencia política pero también de valentía y de responsabilidad para tomar decisiones si queremos conjugar sostenibilidad medioambiental y viabilidad socioeconómica la apuesta por las energías limpias es irrenunciable es en este contexto donde tenemos que situar también la política energética desarrollada por el gobierno vasco

al que no podemos renunciar y es que no tenemos tiempo que perder en este contexto político de cambio

los socialistas vascos consideramos una buena noticia que el gobierno vasco descarte definitivamente apuestas del pasado y redoble su apuesta por energías limpias y coherentes con el contexto

apostamos por una contribución solidaria y equilibrada a los objetivos climáticos que tenemos comprometidos siempre que se desarrollen con garantías en la protección

y que se haga con seguridad y garantía de protección al patrimonio natural proyectos que solo si cumplen con toda la normativa de protección ambiental podrán salir adelante porque insisto no queda mucho tiempo que perder no es el momento de volver a discursos

no es el momento de política de salón el reto al que nos enfrentamos es sin lugar a dudas el más grande y el más importante al que se va a enfrentar nuestra generación a nivel mundial

el grupo socialistas vascos y el grupo nacionalistas vascos quisiera aprovechar la ocasión para agradecer el esfuerzo realizado por los y las representantes de todos los grupos

del partido nacionalista vasco que ha coordinado las negociaciones junto al señor otero de euskal herria bildu agradecer también lógicamente a la señora larrea del partido popular ciudadanos y a la señora gorrotxategi de elkarrekin podemos izquierda unida

no ha podido haber acuerdo pero creo que es fundamental que quede recogido en el diario de sesiones que hemos estado muy cerca

y quiero insistir en una idea fundamental los socialistas apostamos con firmeza por todos aquellos proyectos que redunden en un avance firme y decidido energía descarbonizada y coherente con los compromisos alcanzados tanto a nivel autonómico

pero también dejamos clara la existencia de una línea roja que no debemos traspasar

ya lo he dicho pero lo vuelvo a repetir para que nadie tenga ninguna duda solo si cumplen con todas las normativas de protección ambiental saldrán adelante los diferentes proyectos y ya termino quizá en algún momento podamos volver a abrir el debate sobre el pasado

ver dónde estábamos cada uno de nosotros y nosotras por ejemplo en dos mil nueve

a los socialistas nunca nos ha dado miedo la historia pero ahora en este debate en este que nos trae hoy aquí lo que tiene que quedar claro es que no estamos dispuestos a volvernos a perder una vez más

no podemos permitir que se paralice una vez más una apuesta como la que tenemos por delante nada más muchas gracias eskerrik asko alonso jauna

legebiltzarkideok egun on guztioi bueno comparto en primer lugar la reflexión que hacía

con cierto punto de tristeza porque hay días que parece que rozas el poder llegar a los acuerdos de país a los que se refería la señora gorrotxategi y terminan en una

por parte de la oposición se alterna en las profecías de calamidades

y bueno pues con una serie de declaraciones grandilocuentes como si ellos tuviesen verdad todas las fórmulas y las varitas mágicas

y seguramente en estos cuarenta años

no lo habrán hecho todo bien pero tampoco lo han hecho todo mal tampoco lo han hecho todo mal y hablaba de la historia el señor alonso

ustedes hace diez años no tenían la energía eólica en el frontispicio

no voy a contestar porque no quiero hacer historia sino quiero mirar adelante

en el frontispicio seguro que no tampoco porque hay cosas que con la historia reciente de este país de verdad molestan

con ese tipo de acusaciones y con ese tipo de afirmaciones tan grandilocuentes

a la que hemos echado de menos en muchas ocasiones y en otras ocasiones les hemos echado

de más y a pesar de ello se ha avanzado y desde el punto de vista energético ustedes dirán lo que digan

ochenta porque parece que las energías renovables llevan aquí doscientos veinte años incluso algunos las han descubierto antes

y la vuelta que se le ha dado es para reconocer y no reconocerlo y limitarnos a la crítica es de una injusticia histórica tremenda

como si la vida hubiese empezado en esta legislatura hubiese empezado en los últimos diez años desde el noventa del noventa y cinco me da igual

y a partir de ahí creo que no es el momento de seguir poniendo palos en las ruedas de todo porque en este país

ha habido palos en las ruedas y ahora nos hablan de los frontispicios de los templos griegos hombre por favor dicho esto pues me tocará hablar de mi libro me ha parecido entenderle a la señora gorrotxategi en su primera intervención

oiga pero si luego nos ha hablado usted hasta del anexo uno es decir la política energética de este gobierno creo que es sobradamente conocida en cualquier caso

no le voy a dar más datos sobre lo que es la estrategia porque creo que es de sobra conocida en cualquier caso si no en la segunda intervención

puedo repetir lo que el lehendakari ha planteado aquí en numerosas ocasiones la propia consejera

no es que se va a emitir cero en dos mil cincuenta sino que lo que se emite es igual a lo que se fija en plantas sumideros etcétera no vamos a dejar los humanos de emitir ce o dos no vamos a dejar de producir señor otero

nos piden dos años de moratoria yo no sé si la emergencia climática

son los días pares los impares los jueves no toca ahora vamos a esperar dos años no vamos a esperar dos años hoy se aprueba una ley en madrid que es el maná

para justificar su negativa siquiera a tratarla dice no y nos piden ustedes además que demos nuestra confianza

el parlamento vasco no le pide nada a usted le insta en este caso

a alinear sus objetivos con los del pacto verde europeo para avanzar en un modelo de desarrollo justo y sostenible a través

a usted en este caso no le estamos pidiendo nada no le hemos pedido ese apoyo

pero no ha hablado con nosotros ha venido aquí a explicarnos punto por punto casi punto por punto

que no tendría por qué haber tenido tanto problema insta al gobierno vasco a que la elaboración del plan territorial sectorial de energías renovables se realice con el mayor consenso político y social posible

ustedes escriben lo de social pero la social soy yo hagan lo que hagan no tiene validez

a las medidas medioambientales recogidas en el marco legal vigente así como abrir un proceso de adaptación ah

a la ley de cambio climático y transición energética del gobierno de españa o del señor lópez uralde no sé la señora rivero qué ha hecho estos meses

que vamos a hacer lo que nos pide y tampoco le gusta cuarto lugar instamos al gobierno a que los fondos europeos estatales o vascos de otro lado no creo que lleguen o sea todos los fondos que puedan llegar

se destinen a proyectos de fomento de energías renovables y eficiencia energética siguiendo los criterios de la estrategia energética de euskadi

nos ha faltado poner incluyendo el anexo número primero entonces ese punto

insta al gobierno vasco a que los fondos europeos estatales o vascos destinados a proyectos relacionados con el hidrógeno sirvan para obtener

tampoco esta es la izquierda transformadora la que no coge el teléfono ni se digna a llamar pero viene aquí a decir que hay que hacer un pacto de país la que te dice que no sin haberlo hablado contigo

y más pero ponerse las botas negociar y haber hecho del día de hoy el inicio de ese pacto de país

porque usted ha venido aquí como umbral a hablar de su libro y el mío de momento termina aquí

sobre el hidrógeno que está haciendo precisamente el sector del oilgas para qué para recibir los fondos

fondos públicos para perpetuar las energías fósiles

que nos alerta de que millónes invertidos por el lobby gasístico en europa

que hay millónes invertidos por el lobby gasístico en europa para influenciar y para aprovechar la ola del hidrógeno y tratar de colarnos el hidrógeno gris es decir el que se produce mediante gas pero también quieren además reutilizarlos los sobredimensionados gasoductos y tuberías

mezclado con hidrógeno y seguir el negocio del gas durante muchos años más claro sí efectivamente claro que hay un modelo energético vasco no décimos que no que no haya precisamente lo que estamos diciendo es que parece ser que

lo que no podemos hacer es que el objetivo del gobierno en política energética

treinta años más y que como ahora no puede explotar los pozos de gas porque no es posible que el negocio del gas siga existiendo a través del hidrógeno es eso

efectivamente esto supondría que el modelo energético vasco no tiene nada de nuevo y que son los mismos causantes del oligopolio y los del cambio climático a quienes se les podría querer dar los fondos europeos y vascos para seguir monopolizado la generación de energías renovables y estirando

esa es la cuestión por eso sí pensamos que es muy importante llegar a ese pacto a ese pacto de país

el potencial solar que existe en las cubiertas o los tejados de los edificios pabellones y espacios urbanos de las ciudades

con tres mil seiscientos millónes de beneficios seguro que puede sufragar el sobrecoste de diseñar proyectos en las ciudades y edificios en vez

y no destruir así el medio ambiente y es que creemos que los edificios son la clave en la lucha

es hora también de dejar de construir en euskadi nuevas viviendas dependientes del gas habría que empezar a transicionar viviendas cien por ciento eléctricas con

desde el minuto cero creemos es importante que no dejemos pasar otros

se decía en etb un dato y es que el ocho coma uno por ciento de la población está muy preocupada por el cambio climático entonces ante esta preocupación que es una preocupación extendida de la ciudadanía extender la vida del gas alargar la vida

no parece muy sensato estar invirtiendo fondos públicos en hidrógeno principalmente

o fertilizantes ni para seguir generando negocio para las empresas gasísticas

repensemos cuál es nuestro modelo energético y qué debemos hacer

qué debemos impulsar con fondos públicos y qué no merece ser impulsado con fondos públicos

pero negociemos el modelo energético en este parlamento eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea

señor alonso brevemente se lo dije y se lo vuelvo a decir

ni parálisis por el análisis le pido que me responda dejando la política de salón por favor qué piensa usted hacer

del psoe ha dicho que dos de los emplazamientos que se han escogido por el gobierno vasco y que usted hoy aquí está defendiendo tienen una sensibilidad extrema y no se recomienda hacerlo y me decía

con la normativa ambiental ya ya saldrá adelante con la normativa ambiental y con la licencia social

y lo sabe usted y lo sabe el pnv y lo sabemos nosotros

declaraciones grandilocuentes qué va ez doa hortik es una llamada casi desesperada

más de un noventa por ciento de dependencia energética del exterior

renovables y menos de un diez por ciento de bajada de emisiones de ce o dos en treinta años esos son los datos que le digo yo y esos datos son incompatibles con la autocomplacencia

que usted apelaba a los cuarenta años de trayectoria zuk badakizu

aktitude batzuk behar dituela yo hablo de fracaso sí pero hablo de fracaso colectivo y me incluyo y nos incluimos y creo que nos tenemos que

la responsabilidad no es igual para todo el mundo y quien ha estado en los mandos de la nave en los últimos cuarenta años tiene más responsabilidad que el que no ha estado eso que quede claro

cuando todavía tenemos reciente su caída de ustedes del caballo del impulso a la extracción de gas que afortunadamente hemos dejado atrás palo en la rueda palos en la rueda hablaba de palos en la rueda

en todos los proyectos que han presentado eso es el verdadero gran palo en la rueda ahora mismo para poder avanzar se ha liado

y así lo pone el documento base sometido a participación pública que es necesario un plan territorial sectorial en el ámbito de las energías renovables

también y está subrayado para garantizar que este despliegue se ejecute de forma ordenada planificada respetando los intereses de la ciudadanía y acorde con los valores de conservación de forma ordenada y planificada poner seis y creo que van para siete todavía quedará alguno más

en araba varios de ellos en zonas de especial conservación es ejecutar de forma ordenada y planificada

patas arriba a todo el mundo y este es el palo en la rueda para conseguir que lleguemos a algún puerto hemos negociado tarde y mal con podemos

votemos por separado los puntos porque hay algunas cosas que sí vamos a apoyar vamos a apoyar también la adicional del pp porque creemos que la repotenciación es posible mientras se tramita

hay que bajarse del caballo y es que lo vais a terminar haciendo

o sea no se va a poder poner en marcha todo eso y hemos negociado y no hemos llegado a un acuerdo por una cosa que tiene tela eh tiene tela que es que nosotros decíamos no hablábamos de moratorias

decíamos que no se siga adelante con aquellos proyectos que pueden causar que tienen un potencial ambiental negativo severo eso es lo que no han admitido ustedes ustedes dicen que aunque tenga un potencial ambiental severo se siga adelante

ese es el motivo por el que no hemos llegado a acuerdo y no soy yo

ni es la izquierda loca ni es la oposición intransigente el

el enorme impacto medioambiental y paisajístico y la pérdida de biodiversidad que conlleva dicho parque no compensa la necesaria producción de energías renovables gobernado por el pnv

por el pnv punto dos se pide la paralización del proyecto de montes de iturrieta y hace una relación insisto que no quiero abusar pero onraita troconiz alaiza egileor arrieta mezkia laminoria contrasta gauna sigue sigue sigue dieciocho mil quinientos alegaciones encima de la mesa por favor o sea por favor

porque la verdad me mantengo en pie a base de antibióticos

más fresco pero bueno sabe señor otero que siempre intento responderle otra cosa es que le guste mi respuesta ya vuelve usted con el mapa de miteco el otro día me acordaba de aquellos tiempos donde el señor egibar le presentaba la programa

va a ser usted el que me saque constantemente el mapa

nos gusta trastear inmediatamente con ello obviando o sin leer el libro de instrucciones yo reconozco

pues el otro día trasteando desgraciadamente o desafortunadamente he pasado esta semana bastante tiempo en la cama y trasteando un poco me doy cuenta que efectivamente el miteco tiene también el mapa tiene un libro de instrucciones

y el libro de instrucciones dice exactamente es preciso indicar que el presente modelo el presente mapa no exime de pertinente trámite de evaluación ambiental sigue los valores del modelo no prejuzgan el resultado de una declaración de impacto ambiental pero es que encima lo explica las zonas que presenten una sensibilidad ambiental de menor grado

una resolución ambiental favorable pero insiste de igual manera

no significa que vaya a obtener necesariamente una resolución ambiental desfavorable y concluye es decir

se han de tomar como una recomendación para facilitar una idea inicial a la administración pública que debe realizar la evaluación ambiental de los mismos de verdad

hace verdades de lo que viene de madrid quién lo diría yo estos días me acordaba de aquello que decía

que decía que el archiduque francisco josé anteúltimo

le encantaban los ejércitos se volvía loco le encantaba

ritmo de la marcha radetzky le encantaba sus uniformes

pero sin embargo y paradójicamente a la contra lo que no le gustaba era mandar a sus ejércitos a la guerra porque decía el viejo archiduque

eso pasa un poco cuando escucho algunos discursos de este tipo no muy floridos muy coloridos muy estructurados en la teoría pero que luego

pero que luego a la hora de enfrentarse a la guerra del día a día de la política real de la necesidad de tomar decisiones que es a lo que se dedica un gobierno y es a lo que está este gobierno

tienen el riesgo de ensuciarse su uniforme de bonito discursos que como diría don julio caro baroja son como el café que

pero no alimenta yo creo que es el momento de tomar valentía

y que tendremos que ser valientes dejar estos discursos de salón insisto para tomar las decisiones necesarias que saquen adelante y que sean de estrategia para este país nada más muchas gracias

bai mila esker berriro ere legebiltzarburu andrea señor otero no se lo tome a mal que yo no se lo echo en cara

la posibilidad de negociar le agradezco que el ejercicio intelectual que los dos llevamos durante tres días estoy convencido

para el futuro y que algún día fructificará

ustedes por lo visto siempre aciertan estoy de acuerdo suelen acertar cada vez que corrigen lo primero por ejemplo con la energía eólica

entonces bueno pues démonos tiempo que las cosas siempre pueden mejorar

pero ojo tiene un peligro dice claro no llegamos a un acuerdo

claro nosotros no admitimos eso porque para nosotros es evidente

no tendrá una autorización ambiental y precisamente las alegaciones son parte del orden y del procedimiento ambiental garantista dice hemos presentado cien alegaciones lo que no ha dicho dónde al gobierno más progresista de la historia que es el que tiene que decidir al final cien alegaciones

ha presentado alegaciones claro claro si les digo siempre lo mismo que ustedes nos ven como si fuesemos una especie de espectro que se reúne y hace no oiga mire

que es pública y es privada sobre todo en la parte privada la parte pública está ahí porque tiene interés en desarrollar energías renovables la parte privada está ahí

porque tiene interés en invertir y sacar un rédito de eso porque las empresas

y cada empresa a la medida de sus obsesiones y van a eso y luego qué pasa que estamos los ayuntamientos y estamos las diputaciones y están los partidos

cada uno en su sitio para decidir en qué condiciones se puede hacer en qué condiciones no se puede hacer

y su mapa y la ministra cuando lleguen ustedes han pedido aquí veinticuatro aquí y aquí y aquí

no se puede hacer y entonces la empresa tendrá que decidir de los veinticuatro que he pedido me dejan hacer doce me sale no me sale lo hago no lo hago y nosotros en ese sistema creemos y además

nos acusan de poner palos en las ruedas cuando

porque han solicitado cinco permisos hemos montado un circo tremendo se nos ha sublevado un montón de gente

cinco permisos para empezar a hacer una política de renovables seria de una vez por todas en este país

si lo hacéis mal adrede o qué

tampoco creo que sea muy complicada tienes que viajar una horita de coche

con cinco permisos cuando en nafarroa en este momento se están tramitando noventa y tres noventa y tres

ustedes chito ustedes chito no sé por qué lo hacemos tan mal o qué hacemos tan mal o qué diferencias hay entre

la legislatura pasada y unas cuantas antes había un parlamentario que se sentaba más o menos por allí que solía decir o decía que no entendía

que le quisiesen o que le llamasen neoliberal

liberal a carta cabal entonces es únicamente para decirles que no acabo de entender su enmienda de hoy señor

es decir somos liberales los días pares los días impares

somos liberales intermitentes liberales mediopensionistas porque de verdad

ojo que como idea me parece muy buena pero no sé si en el ideario liberal encaja muy bien eskerrik asko eskerrik asko grajales jauna

miembro del gobierno presente señorías la pasada semana se presentó ante esta cámara una interpelación al señor consejero de economía y hacienda al

don pedro maría para los amigos relativa al plan de reformas que se ha enviado

la preocupación fundamental que tenía este parlamentario nuestro grupo y entiendo que sobre todo gran parte de los componentes de esta cámara y de la propia sociedad

la gestión de este importantísimo plan que está compuesto por una serie de medidas que tienen que ser proyectos ciertamente transformadores de la economía de la que pende no solamente la propia economía española y europea sino el bienestar ya no solo de nosotros sino de las generaciones futuras esencialmente la propia reglamentación de la unión europea establece que antes de establecer los proyectos que van a ser financiados

lo que hay que hacer es consensuarlo con las autoridades locales y autonómicos o regionales que existen en los estados miembros lo que ha sucedido es que eso

hasta por dos veces ante el pleno de esta cámara no ha sucedido eso no sucedió eso no sucedió

la necesidad de tener que hablar consensuar ciertas medidas con las comunidades autónomas en un estado

con un gran nivel de descentralización y competencias por parte de las comunidades autónomas es muy importante por qué porque señorías como usted sabe nada es gratis y en este caso

a la realización de una serie de reformas muy importantes reformas que tienen que ver con ámbitos competenciales con algunas cuestiones por ejemplo con la cuestión fiscal en la que en nuestro caso pues las diputaciones forales por ejemplo tienen competencias muy importantes

de políticas de empleo también hay competencias autonómicas cuestiones muy importantes de mercado interior por supuesto es decir el gobierno

ante todos ustedes señorías se van a presentar por parte del gobierno proyectos de ley de modificación del actual ordenamiento es que va a ser necesario que aprobemos en esta cámara algunas medidas importantes medidas

estas reformas y garantizar así que cumplimos con nuestra parte

de este parlamentario del grupo y entiendo que de gran parte de los miembros de esta cámara es por eso

interpelación y las explicaciones que dio el consejero azpiazu en ese momento pues se presenta o se presentó ante el registro y presentamos ante esta cámara una moción

que incluye fundamentalmente tres elementos que incluye fundamentalmente tres elementos que ahora pasaremos a reseñar esos tres elementos sobre todo

con que se consensue con las comunidades autónomas y por supuesto con la nuestra con euskadi la forma en la que se van a ejecutar estos proyectos y las que va a venir esta financiación europea y sobre todo que se respeten las propias competencias y que se diseñe conjuntamente esos planes de control

y también lo que son las políticas de evaluación de efectivamente proyectos y gasto público

para defender esta propuesta si me permiten señorías y aunque no está aquí presente pero como suele decir el parlamentario señor alonso es muy importante previamente

en tres puntos principales primero cuál es el contexto cuál ha sido esta la actitud del gobierno de españa

también sino sobre todo en aprender de lo que ha sido la actuación por parte del gobierno de españa en segundo lugar la propuesta que

y en tercer lugar también qué es lo que no se debe hacer una mirada al futuro qué es lo que no se debe hacer cuando se están gestionando fondos europeos y sobre todo cuando

de una estructura en la que todos sus integrantes tienen que estar perfectamente coordinados gobierno central gobiernos autonómicos en nuestro caso también las diputaciones forales incluso las entidades locales miren básicamente en cuanto al primer punto lo que ha sido la actitud del gobierno de españa hay dos puntos principales hay dos puntos principales que yo creo que en esto el propio gobierno vasco al menos el señor azpiazu sí que nos dio o sí que me dio el otro día la razón me la dio además demasiado lo cual empezó a preocuparme porque me estaba dando demasiado la razón

las reformas que se han enviado a bruselas el paquete de reformas de propuestas de compromisos para cambiar ciertas cuestiones que tienen que ver con el empleo con el mercado interior con pensiones etcétera

y manifiestamente inconcretas ahí se habla de una reforma laboral

anterior reforma laboral si no se va a derogar de qué manera si vamos a financiar el coste de la derogación de la reforma laboral con fondos europeos por lo tanto cargando aquí a gastos estructurales esa política en el tema de la reforma de las pensiones es algo que también se tiene que analizar y que no está específicamente definido como

la reforma fiscal en la que tampoco se establece exactamente no queda bastante bien definido cómo va a acabar el equilibrio entre ingresos y gastos porque cuando uno gasta más o quiere gastar más o bien sube impuestos o bien realiza reformas estructurales de importancia cosa que tampoco ha sido convenientemente explicado no lo digo yo que podría decirlo

y el segundo argumento el primero es la falta de concreción de estas medidas que se han mandado a bruselas

por supuesto esta falta de diálogo a la hora de definir y de

las políticas públicas a la hora de definir las inversiones y las reformas de este programa que además se le ha puesto españa puede y que ciertamente violan lo que ha sido violan lo que ha sido o lo que está establecido en el propio reglamento de la unión europea como decía hasta en dos ocasiones el consejero de economía confirmó aquí que no se tenía conocimiento del plan de reformas por parte del gobierno vasco antes de ser enviado a bruselas

un elemento a disposición de cualquier afectado para presentar eventualmente

se pone en riesgo la llegada de los fondos europeos y es necesario nosotros hemos sido muy críticos con la forma en la que se ha establecido todo esto en la forma en la que se han gestionado

eso ya desgraciada ese punto ya pasó somos críticos pero es que ahora el punto lo que se trata es de salvar la situación que puedan venir los fondos europeos y que sobre todo se puedan llevar a cabo una serie de políticas necesarias transformadoras para la economía que es algo que a la economía española a la economía vasca le cuesta mucho hacer auténticas reformas transformadoras y está por supuesto el tema competencial está por supuesto el tema competencial no se han tenido en cuenta la estructura competencial que tiene españa en materia de impuestos ya no solamente pues con por ejemplo con el caso nuestro con euskadi con las diputaciones forales ni tampoco con navarra ni tampoco al régimen específico que puede tener canarias etcétera

ha sido consensuada y ha sido acordada

su interés y el esfuerzo por que intentemos llegar a acuerdos porque esencialmente la enmienda que presentó se presentó y la que presentábamos nosotros era sustancialmente idéntica o al menos

en primer lugar como decía es muy importante consensuar los criterios de aplicación es muy importante respetar el reglamento en lo que se refiere establecer un proceso de consulta con las autoridades locales y regionales es que no se trata simplemente de una deferencia no se trata de notificar lo que se va a hacer se trata de acordarlo por qué vuelvo a insistir porque es que tendremos que hacer reformas tendremos que modificar el ordenamiento jurídico de la comunidad autónoma de euskadi para poder

por parte de la unión europea por eso es necesario ese consenso esto sería un buen ejemplo de cogobernanza en lugar de palabras así simplemente vacías que luego a la hora de la verdad no llevan a nada también es necesario por supuesto que los compromisos sean reales se puedan llevar a cabo pero sobre todo

se establezcan una serie de medidas y en esto la unión europea es tremendamente exigente cualquiera que haya gestionado proyectos europeos de cualquier nivel en mi caso esa ha sido mi experiencia sabe perfectamente que a la hora de gestionar fondos europeos

efectivamente la unión europea es muy exigente como debe ser con dinero público y además conmina siempre a las partes que reciben subvenciones

o de detección de casos de corrupción y defraude importantísimos sino también muy importante de evaluación de las políticas públicas porque a medida que se van ejecutando ciertas políticas públicas si no las evaluamos no sabemos cuál es el resultado real y no podemos por tanto a aprender de nuestros propios errores por eso entendíamos que era importante incluir también esta cuestión en nuestra propuesta hasta aquí la propuesta que se presenta a esta cámara y que insisto ha sido consensuada con los dos

que esencialmente recoge lo que se contenía en la propuesta original en tercer lugar qué es lo que no se debe hacer vamos a aprender de los errores qué es lo que no se debe hacer lo que no se debe de hacer nos lo vino a decir recientemente en un informe

qué es lo que ha establecido la airef por cierto una agencia independiente era tan independiente que el presidente del gobierno decidió nombrar al anterior presidente ministro pero claro

en primer lugar el plan de estabilidad establece el informe

ni ningún plan para reconducir la deuda hacia la senda de la sostenibilidad

la deuda propia específica de euskadi pues sí que es verdad que está en unos niveles por debajo de los que son los niveles nacionales pero lógicamente también participamos de lo que es el común de la deuda nacional que también nos acaba afectando a la hora de calcular previsiones económicas y demás por tanto

en ese plan que ha mandado el gobierno a bruselas en segundo lugar el gobierno es que lo fía todo al plan de recuperación nosotros aquí le hemos criticado

en el caso de su homólogo o de su homóloga en este caso en el gobierno de españa lo fía casi todo al plan de recuperación que incluso ya han incluido en los propios presupuestos y una cosa muy grave relacionado con esto

porque se pretende o eso parece según ha analizado la propia airef que se pretende imputar

con fondos europeos cosa que no puede ser cosa que no está permitida por la regulación de estos fondos

el informe del airef y esto ya es una interpretación pero yo creo que la mayoría o al menos

todas sus señorías aquí presentes lo pueden compartir es que

de la publicidad institucional por no hablar de la propaganda institucional está bien que los gobiernos establezcan y comuniquen con palabras sencillas y sobre todo

para comunicar de una u otra forma menos impactante lo que tienen pensado hacer pero hombre yo creo que ya el gobierno nacional en esto se ha pasado de la rosca muchísimas veces

y esto es uno de los puntos principales que existe un alto riesgo de convertir en estructurales

una línea que no se debe cruzar es decir no se pueden utilizar los fondos europeos

ni para tampoco establecer unos gastos estructurales que van a ser permanentes porque lo que puede pasar que lo ha detectado el airef es que cuando acabe esto cuando acabe la ejecución de estos fondos

un punto más de déficit estructural después de haber recibido ciento cuarenta mil millónes de euros eso es lo que no pueden ser insisto lo que no puede ser es que después de todo este esfuerzo

al final acabemos teniendo más déficit estructural

por eso señorías esta propuesta que hoy se plantea ante esta cámara lo que pretende sin más es instar al gobierno de españa básicamente

ya que no quiso consensuar con las comunidades autónomas la forma en la que se iban a seleccionar los proyectos ya que no quiso consensuar tampoco la reforma sobre todo

las reformas que se iban a hacer por lo menos que se consensue la forma en la que se van a acabar ejecutando los fondos europeos muy importante y esto es fundamental hay que tener en cuenta hay que introducir

a las entidades locales hay que introducirlas en esos mecanismos de intercambio de información porque ellas van a tener que llevar a cabo la reforma y el punto tercero y con esto finalizo señorías es que tenemos que aprovechar también esta oportunidad para introducir la cultura de la responsabilidad a la europea en el gasto público y sobre todo de la evaluación de las políticas públicas por esto señorías les pido hoy el apoyo a esta

eguerdi bidean ja me resulta casi enternecedora señor gordillo que

que tanto hueco político se intentaron hacer en españa a base de criticar las competencias la fiscalidad

está muy bien verle hacer esta defensa férrea de nuestras competencias y de nuestra fiscalidad

pero bueno en cualquier caso esa parte es bienvenida guk europako funtsen inguruan

egiten du es curioso de hecho que una interpelación que tenía dos líneas de argumentación o de ataque se haya convertido en una sola en mirar a madrid y no a lakua pero usted

y cito del diario de sesiones y mirando a lakua decía se podía haber hecho mejor las iniciativas que se han presentado son superficiales

ha faltado un concurso competitivo sobre los proyectos a presentar ha habido falta de priorización de los proyectos falta de debate la definición de proyectos creo que es muy

errores asimetrías faltas de coordinación sectores que se quedan fuera y les dijo el gobierno español está haciendo ahora con ustedes lo mismo que ustedes hicieron aquí con la oposición

hablaba de la inclusión de expertos a propuesta de grupos parlamentarios en la elaboración de los planes eta gu ados egon gintezke hor egiten ziren hainbat apreziazioekin

a realizar en clave de encomiendas de gestión incluso para políticas públicas que son competencias exclusivas ba hori hori kontua da honi aurre egiteko

eta esaten zuen en todo caso podremos intentar que el estado asuma como propias esa inversión eso decía

ha pasado si un gasto que se lleva ejecutando el de la red de alta velocidad durante más de veinticinco años no es un gasto ordinario

ustedes me dirán sobre esto sin embargo no creo que nadie diga nada no creo que nadie se queje erreformen inguruan ere asko dago esateko

como pretende el gobierno vasco elkarlanerako

interpelazioan azpiazu jaunak bost aldiz hitz egin zuen horretaz bost aldiz literal todos los partidos aquí presentes debemos aunar esfuerzos

proceso otra nosotros estamos dispuestos a trabajar con todos ustedes de forma intensa

una vez más a usted y a todos los grupos de la cámara a que se sumen a este reto colosal que tenemos por delante

y volvemos a traer la petición de la creación de manera urgente de una oficina estratégica y si quieren lo pueden llamar como quieran donde nos podamos sentar a hablar de esta colaboración que se supone que

nos está poniendo sobre la mesa azpiazu hablaba de que han podido leer en los medios las cosas como si no se les estuviera diciendo de primera mano no como nosotros

para el diseño de esto en serio en serio hay preocupación por el diseño que se está haciendo en españa no digo que no haya

ustedes qué tienen para aportar quién ha hecho aquí el diseño de los proyectos las empresas consultoras que acaban de ser sancionadas por

quién le ha ido dando forma a todo eso nosotros proponemos la creación

las propuestas con intensidad como decía el señor azpiazu en sus manos queda en cualquier caso eskerrik asko otero jauna euskal sozialistak

gracias presidenta consejeros señorías efectivamente el pasado

en el que se planteaban los objetivos generales y la coherencia del plan en base a las inversiones y reformas

componentes la complementariedad la implementación la gobernanza el proceso de consulta y el control las auditorías del plan

del mismo y la comparación con el escenario base de inversión para su evaluación en un plazo de dos meses ayer saltaba la noticia de que para la segunda quincena de julio

es evidente que urge poner en marcha este plan de inversiones y reformas con un triple objetivo

impulsar a medio plazo un proceso de transformación estructural

un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico financiero social territorial y medioambiental

proporcionan una ocasión extraordinaria para desarrollar el plan y contrarrestar así el impacto de la pandemia sobre la inversión y sobre la actividad económica en españa y en las comunidades que la conforman de aprobarse el plan

en el período dos mil veintiuno dos mil veintiséis que se unirán

para impulsar las inversiones y las reformas en los ámbitos prioritarios a nivel europeo el plan se centra en la primera fase de ejecución y detalla además las inversiones y reformas para el período dos mil veintiuno dos mil veintitrés movilizando cerca de setenta mil millónes de euros en transferencias

con el fin de impulsar la recuperación y lograr el máximo impacto contracíclico el plan está estructurado en torno a las cuatro transformaciones que el gobierno de españa ha situado desde mediados de dos mil dieciocho en el centro de la estrategia de la política económica

la igualdad de género y la cohesión social y territorial esos cuatro ejes se proyectan en diez políticas palanca de gran capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo

y se desarrollan en treinta componentes que derivan en ciento diez inversiones y en ciento dos reformas y me voy a centrar en los tres ámbitos que planteaba en su moción

el cumplimiento del reglamento de creación del mecanismo de recuperación y resiliencia el plan de reformas y el sistema de control del plan y los socialistas vascos consideramos que el gobierno de españa ha cumplido en la elaboración del plan el reglamento del parlamento europeo y del consejo de doce de febrero de dos mil veintiuno por el que se establece

ha cumplido con todos y cada uno de los setenta y cinco considerandos y con los treinta y seis artículos y los ocho anexos en el propio plan se detallan los procesos participativos

de la elaboración del plan la participación de las distintas instituciones públicas y grupos políticos

y el tejido empresarial bajo el convencimiento de que solo mediante el diálogo y la colaboración se pueden diseñar reformas e inversiones con el potencial

diversos espacios de consulta con el fin de recoger las propuestas y las opiniones de todos los actores relevantes de los agentes sociales

de las instituciones y de las organizaciones representativas de cada sector implicado las empresas potenciales beneficiarias del plan y también cómo no de la ciudadanía en su conjunto de todo eso hay foros en el capítulo cuarto

especifica el diálogo con las comunidades autónomas habiéndose creado una conferencia sectorial del plan de recuperación transformación y resiliencia

presidida por la ministra de hacienda con el objetivo de establecer los mecanismos de coordinación del mecanismo de recuperación y resiliencia y que ha mantenido

los distintos ministerios han activado sus respectivas conferencias sectoriales

un cauce directo de información y participación de las comunidades autónomas en las decisiones del plan se han celebrado siete se han realizado veintitrés consultas sectoriales en los foros de alto nivel y consejos consultivos

han sido quince las invitaciones a manifestación de interés como un procedimiento además similar al de consultas que tiene la unión europea para involucrar precisamente

en el diseño del plan el gobierno vasco en el ámbito de la automoción por ejemplo lo dije en un anterior debate ha presentado dos manifestaciones se ha presentado a dos manifestaciones de interés

se basa en las recomendaciones específicas para españa dentro del semestre europeo dos mil diecinueve y dos mil veinte y está alineada con las agendas estratégicas desplegadas

hay veinte que representan acciones diferentes para reforzar y modernizar los ámbitos principales que condicionan la estructura económica y la trayectoria también económica del país a través de los treinta componentes del plan se recogen las reformas transformadoras que van a reforzar el impacto de las inversiones concretadas en cambios normativos modificación y revisión de procedimientos administrativos o incluso actuaciones concretas de las distintas administraciones

y algunas están específicamente dirigidas a impulsar la modernización de los sectores tractores como el comercio el turismo el sector agroalimentario la salud la automoción

en cuanto al control y la auditoría tal y como se señala en el capítulo cuatro punto seis de ese plan en la línea de la respuesta dada por el presidente del gobierno a la señora a arrimadas el pasado catorce de abril en el congreso de los diputados con el fin de

que responda a los más altos estándares de control y auditoría se plantea un marco completo de control y de información en colaboración además desde el primer momento con la comisión europea el sistema de control es totalmente diferente del que ha venido resultando de aplicación en los fondos estructurales y el resto de fondos europeos de gestión compartida porque el propio plan se separa la gestión de estos fondos

que va a descansar en los sistemas de control que ya existen en las administraciones públicas así se desarrolla explícitamente en el plan

el control interno del órgano independiente el régimen de auditorías y controles

las auditorías sobre las solicitudes de pago enviadas a la comisión las auditorías sobre las medidas para prevenir detectar y corregir el fraude

que en este caso además se va a basar en la metodología prevista en el ámbito de control de los fondos estructurales sobre la cuestión auditoría sobre la doble financiación

auditorías de legalidad y regularidad del gasto basadas en los sistemas nacionales de control

de lucha contra el fraude se establece también en ese plan quiénes son las autoridades responsables en el control del plan y los medios que se asignan para su control

para impulsar y coordinar acciones que favorezcan un óptimo desarrollo tanto del plan de recuperación transformación y resiliencia

esta enmienda a la que hemos llegado a un acuerdo que lo que pretende en definitiva es manifestar como dice el gobierno la total compatibilidad

de recuperación transformación y resiliencia con sus diez políticas palanca y treinta componentes con las ocho componentes que conforman el programa

considerando además que hay compatibilidad entre los siete ámbitos emblemáticos establecidos por la unión europea y el plan de recuperación transformación y resiliencia

recoge la relación entre sus ocho componentes y los treinta del plan del gobierno de españa el alineamiento existente es verdad que la elaboración del plan ha sido compleja que su ejecución va a ser todo un reto histórico y que va a poner a prueba a las administraciones a los agentes sociales y al propio tejido productivo mire decía el señor

se trata de no echar más leña al fuego sino de impulsar el refuerzo de los mecanismos de diálogo para poder negociar para poder

todos mucho se trata de configurar el camino y orientar la política hacia el acuerdo hacia el diálogo y sobre todo hacia la negociación gracias

que hoy tengamos la oportunidad de debatir un asunto determinante para el futuro de nuestro país

lo debatimos además en un momento clave en el que las instituciones europeas tienen que pronunciarse sobre la propuesta enviada por el gobierno español y decidir si se cumplen o no los requisitos establecidos para acceder a las ayudas

muchas de las expresiones que ha utilizado consensuar colaborar participar escuchar a las instituciones a las más cercanas que son las que después deberán gestionar

son el instrumento más relevante y ambicioso de todos los recogidos en este en este plan

la pandemia de la covid diecinueve ha golpeado a la unión europea

y sin que la fase de recuperación dos mil trece dos mil diecinueve hubiera conseguido corregir el rumbo hacia un crecimiento inclusivo y uniforme

insuficiente agravando parece ser su duración y profundidad en esta ocasión el diagnóstico ha sido acertado y el instrumento en su diseño está a la altura del desafío de ahí que también este giro me recuerde o nos recuerde supongo a más de uno al momento hamiltoniano en estados unidos ya que

tal y como lo hizo hamilton cuando unificó la deuda de los territorios en los primeros compases de estados unidos

que busca sentar las bases del progreso y la prosperidad de la unión europea para las siguientes generaciones y de ahí la orientación también de dicha iniciativa afrontar el reto de la transición energético ecológica

como palanca para la modernización de la unión europea y euskadi cuenta con las herramientas para avanzar en esta senda es competitiva tiene una industria avanzada

público privada que está funcionando euskadi está hoy en una posición de salida aventajada y debemos aprovechar este posicionamiento para la transformación una ejecución exitosa del next generation es una oportunidad para impulsar yo diría

la primera la del cincuenta y nueve tras el plan de estabilización y la segunda con la entrada en el ochenta y seis en la entonces comunidad económica europea

aún no formando parte de los fondos estructurales que dan forma a la política de cohesión europea que podría ser otra alternativa de gestión que ya ha propuesto el gobierno vasco puede ejercer

a la vez que preservar el mercado único y asumiendo la doble transformación mencionada españa ha denominado el plan

como el plan de recuperación transformación y resiliencia españa puede y el término transformación aparece así en el frontispicio del plan de forma acertada

recuperación a través de todos los programas que por ejemplo el gobierno vasco está ejecutando para evitar el colapso económico financiero y salir a flote pero sin embargo este plan europeo debe de ser un plan de futuro para las siguientes generaciones y debe servir de palanca para la transformación

el plan español debe ser diseñado y consensuado con las comunidades autónomas cumpliendo con lo que el propio reglamento del

de ahí que la enmienda que hemos presentado y que ello ha llevado a llegar a un acuerdo con el grupo proponente inste al gobierno de españa

considerando particularmente el marco competencial de euskadi y si valorásemos esta línea de cogobernanza y codiseño euskadi plantea varias ideas como pueden ser entre otras por ejemplo solicitar la distribución de los fondos por ministerios

también exigir una mayor consideración de las estrategias de especialización inteligente impulsadas por la unión europea exigir una mayor consideración de las políticas públicas desarrolladas

y las actuaciones que se van conociendo porque básicamente la no consideración de dichas políticas puede acabar vulnerando el principio ya comentado en esta sesión el principio de adicionalidad previsto también en el considerando veinte del reglamento del mrr más aportaciones apurar los plazos de ejecución

o la definición de los perte regionales que tal y como ya adelantó el sailburu azpiazu en este parlamento se prevén incluir en la siguiente la versión del programa euskadi next a aprobar este mes

sí cumplen con el resto de requisitos de los perte en cuanto a carácter estratégico transformador competitividad global de desarrollo tecnológico de vanguardia etcétera

presentamos nuestra enmienda cara a una mayor colaboración consenso codiseño con el gobierno de españa porque de lo contrario existiría el riesgo cierto también así concluye

que de no aprovechar todos los fondos europeos de centrarse en exceso en el corto plazo

de no ser capaces de asociar al sector privado e invertir de manera insuficiente porque hay que ser capaces de separar el grano de la paja y todo dependerá de la solidez del esquema institucional de la toma de decisiones y cómo se reforma en qué se invierten los recursos de cómo se aborde este desafío institucional de gestión coordinación codiseño y cogobernanza y ante todo ello es fundamental el papel de las regiones como euskadi el pasado lunes mencionaba eneko landaburu en este parlamento en una jornada sobre el futuro de europa

por su trayectoria por su capacidad propositiva tiene un aval y una clara credibilidad y posición en europa por tanto debemos potenciar nuestras fortalezas

las sinergias porque sin una cogobernanza real existirá el riesgo de perder el tren porque países como alemania polonia o los países escandinavos no estarán dispuestos a mutualizar la deuda como en esta ocasión

debemos poner todo nuestro empeño y trabajo en el mejor diseño implantación y ejecución de los fondos y para ello euskadi debe tener un papel fundamental

en primer lugar agradecerle la oportunidad que nos brinda al traer una iniciativa de este calado porque

tendremos ocasión de hablar de una cuestión tan importante y estratégica para el país como son

pero también permítame decirle que la verdad es que la iniciativa en lo que ha quedado es decir en la transacción aunque la original era prácticamente igual

grandes novedades porque los representantes de los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno vasco

lo mismo en este sentido lo que se pide en este texto ya se hace

no le vemos gran fundamento a la cuestión básicamente porque

a relatarle pero tampoco con tanta profusión como ha hecho la representante del partido socialista ya que ya se ha dicho prácticamente todo pero ya le digo que los instrumentos que permite lo que ustedes piden pues están en marcha

a euskadi y a lo que tiene que ver con los fondos europeos en relación con euskadi es verdad que los fondos europeos

y de futuro para conformar los pilares y las palancas que nos van a permitir además de recuperar lo perdido también y en esto luego

el tejido productivo del país a nivel estatal y también reforzar que tal vez sea lo que a consideración del partido nacionalista vasco no se hace reforzar aquellos elementos que ejerzan de palanca en la economía tanto vasca como española

que en ocasiones se ha considerado que los fondos europeos

y no tanto a hacer una transformación de la economía para las próximas décadas en cualquier caso decir

es evidente y que en ese sentido nuestro papel como en el gobierno de coalición procurará ser lo suficientemente responsable como para tener una altura de miras y no quedarse en el cumplimiento de los equilibrios presupuestarios de los próximos ejercicios sino que vaya algo más allá si no será desde luego una oportunidad perdida también decirle

sorprendente o un tanto cínico que aquellas formaciones políticas que vienen aquí permanentemente a insistir en la necesidad de la baja de los impuestos que suelen

como un gasto permanente que no contribuye a mejorar la economía ni que lo público deba de tener un liderazgo en la recuperación económica luego vengan aquí a en fin erigirse en grandes defensores de lo que es

que en este sentido pues bueno queremos hacer un paralelismo aunque

nada que ver una contradicción con lo que sucedió en la crisis del dos mil ocho y cómo se abordó la crisis del dos mil ocho por parte de la formación política

es verdad que en los primeros años también el partido socialista participó de esas dinámicas pero en cualquier caso decirle que después el partido popular recordemos los viernes negros de recortes en los consejos de ministros y de cómo desmembraron el estado

y las dificultades del tejido productivo para salir adelante en este sentido el modo en el que a nivel europeo se pretende abordar la recuperación económica fruto de esta crisis

alegrarnos de que desde luego no sea en los mismos términos en los que se hizo en el pasado

que figuran en el plan que se presentó por parte del gobierno de españa porque ya se han mencionado pero decirle que en principio

sectorial del plan de recuperación así como las conferencias sectoriales por parte de ministerios y también las distintas manifestaciones de interés creemos que ahí existen

podrían ser desde luego más de los que hay pero los hay

a la cuestión del tercer punto suscrito que tiene que ver con

elementos de control y de auditoría pues lo mismo en principio la intervención general de la igae realizará estas auditorías por mediación de la oficina nacional de auditoría

ya yendo a la cuestión de euskadi sí que creemos que en fin podríamos compartir bastantes elementos que el gobierno vasco está tratando de impulsar en su negociación o diálogo con el gobierno de españa pero creemos que la verdad es que

a nuestra formación política en euskadi ya digo hubo un pleno monográfico que bueno si ese no era el espacio para el gobierno pues podría haber sido otro pero desde luego en el pleno monográfico que hubo ninguna de las sesenta y seis resoluciones que presentamos ninguna

se aceptó criticamos el modelo de participación municipal en la identificación de los proyectos estratégicos de euskadi en cuanto a que

gobierno vasco y con bueno desde luego sí con el partido nacionalista vasco

con un carácter más de palanca que de en fin que de equilibrio presupuestario y de salvar las caídas del pib fruto de la crisis económica y en este sentido

nos brindamos a la colaboración en este sentido y a que el modelo utilizado por parte del gobierno vasco y de los partidos que le sostienen a la hora de trabajar la cuestión de los fondos europeos por parte de nuestro

sea distinta y en este sentido ya le digo que respecto a la propuesta que han transaccionado finalmente pues nuestro grupo votará favorablemente pero básicamente votará favorablemente porque es lo que ya se hace es decir

no podíamos votar en contra porque básicamente interpela al gobierno de coalición y a los mecanismos de participación que este ofrece y respecto a euskadi básicamente no dice nada entonces en este sentido

a la iniciativa y en cuanto a la propuesta de eh bildu nos abstendremos porque aun considerando que deben de haber mecanismos a nivel de euskadi pues que permitan hacer algo como mínimo parecido a lo que se está haciendo a nivel

pues creemos que existen además de la planteada por eh bildu más fórmulas de participación en cualquier caso como ya hicimos en anteriores ocasiones pues nos abstendremos porque pues respecto a la oficina que no se está aplicando el mismo mecanismo a nivel del gobierno

gracias señora presidenta bueno y gracias a todos los grupos por sus intervenciones

en el tema de las inversiones y yo creo que ninguno o casi ninguno ha hecho ninguna referencia al tema de las reformas y sobre todo de las garantías que establece esta propuesta para que se lleven a cabo las reformas no sé si es que no les gusta hablar del tema de las reformas o es que no les gusta darme la razón como sí le gusta al señor azpiazu darme la razón de vez en cuando pero hombre yo creo que aquí podemos

estaba redactada para alcanzar el mayor consenso posible en esta cámara y sobre todo efectivamente mandarle en este caso un mensaje al gobierno de españa que es el que

no ha habido una comunicación un consenso previo un acuerdo previo a la hora de plantear los que iban a ser los proyectos que se iban a enviar ni las reformas tampoco es decir es que no ha habido

pero ha habido una comunicación ha habido una negociación ha habido un consenso no sobre las inversiones que ha habido mediopensionista sobre las reformas no la ha habido es que no la ha habido lo ha dicho aquí el señor azpiazu dos veces es que no la ha habido por eso me extraña eso que me dice

yo no sé si es que se ha centrado usted solamente en la parte de las inversiones pero es que esto no se hace la parte no se ha hecho la parte de las reformas que insisto es que esto es lo grave lo realmente grave es esto

o cómo se lo van a vender sus distintos votantes pero es que lo importante aquí es ver cómo va a quedar esto a largo plazo y cuáles van a hacer esas reformas necesarias pero bueno hoy por lo menos no me han llamado bueno me han llamado cínico

se refería antes a mí por el señor garrido yo soy gordillo garrido es otro es

al gobierno vasco pero vamos que hombre vamos me declaro liberal vamos sin ningún problema en todo caso que no dice nada sobre euskadi

retira el apoyo pero hombre claro que se dice se dice que se respeten las competencias

federal una estructura de una estructura de una división sensata racional de competencias donde

pero vamos cuando quiera que hablemos de fiscalidad de verdad hablaremos aquí de fiscalidad de verdad y esa es la propuesta la propuesta nosotros hemos sido muy críticos y ya por terminar con lo que fue el proceso del establecimiento o la concreción

y cuáles iban a ser esas inversiones hemos sido muy críticos en todas partes gracias a que intervenimos

y como ya lo hemos visto y ya hemos padecido lo que implica esta falta de consenso esta falta de un acuerdo

se presenta esta propuesta que es precisamente para evitar que lo que ha pasado con las inversiones vuelva a pasar con los programas

o con las iniciativas que luego vendrán de reformas estructurales y reformas jurídicas que va a haber que establecer y que vamos a tener que pasar

y aquí tendremos que aprobar algunas de ellas que las diputaciones forales habrá que aprobar otras de ellas en el congreso de los diputados

así es como funciona y por eso se presenta esta iniciativa pero yo agradezco sinceramente el apoyo en cuanto

a la enmienda que ha presentado el señor otero estando de acuerdo en que va a ser necesario un sistema de control y de gestión efectivamente y fiscalización de cómo se va a realizar esto lo que es el gasto y lo que son también

y que los grupos parlamentarios puedan estar convenientemente informados de algo tan importante como esto pero por eso votaremos en contra aunque creo que es interesante que se presente en otro momento una iniciativa

tanto de las reformas como de la ejecución de las inversiones muchas gracias a los grupos

zaigu legebiltzar honetan honetarako gaudela o sea política española completa

se trata de repente en este parlamento de dirimir sobre si el gobierno de españa lo está haciendo bien mal o regular y de paso nos escaqueamos de lo que estamos haciendo porque vaya procesito de euskadi next que llevamos kuriosoa da

onartuko den proposamenaren lehendabiziko puntuan se habla del reglamento

y se habla del artículo veintiocho y del artículo dieciocho que hablan de cómo se tienen que hacer estos planes

han dejado la recomendación o el reglamento lo han dejado cortado que es muy significativo como se ha hecho se hablaba

del plan y el artículo dieciocho punto cuatro del reglamento en su apartado r habla

de las autoridades locales y regionales pero no para ahí el reglamento no para ahí el reglamento dice autoridades locales y regionales los interlocutores sociales las organizaciones de la sociedad civil las organizaciones juveniles

y pertinentes esa parte no nos interesa señores del pp ciudadanos eaj

y podemos que están en las mismas esa parte ya no interesa tanto no

del resto ya si eso dónde están las organizaciones juveniles dónde están las organizaciones sindicales dónde están las organizaciones políticas en el proceso del euskadi next no lo va a decir nadie vamos a dejar el reglamento

el informe de fedea que me parece especialmente interesante fedea la fundación de estudios de economía aplicada

como consideración general sería deseable que la selección de políticas y proyectos tuviera un carácter transversal al arco parlamentario

y es de esperar que el impacto de esos programas sea mucho más duradero abarcando diferentes legislaturas y gobiernos

tienen la responsabilidad de establecer acuerdos acerca de la definición de programas y políticas en el marco establecido por la unión europea con el compromiso de mantenimiento de los mismos no es lógico

pueda ser un acto de gobierno de ningún gobierno que es justo lo contrario de lo que está haciendo este gobierno

en alguno menos pero los mismos básicamente eta ez du balio gero kolaborazio eskaintza permanente bat eduki colaboración vendo y para mí no tengo horrela

gracias presidenta vamos a ver señor gordillo su interpelación

y repartió estopa al consejero y a su equipo con términos como desorden despropósito desfase entre planes información parcial del euskadi next

falta de debate falta definición en los proyectos han ido a su bola no han priorizado proyectos gestión descoordinada de los planes

olvido de sectores y una gobernanza del plan que deja mucho que desear si quiere usted empatizar conmigo yo le rogaría desde el afecto y respeto olvídese

discrepancias es verdad que los fondos europeos por la significación que tienen por la importancia que tienen muy complejo tanto en retos como en inversiones como reformas que suponen tanto para el plan como para el euskadi

sí va a haber diversidad de opiniones sí va a haber roces sí

en los órganos de participación y consulta porque allí es donde cada uno

y entendiendo que las comunidades autónomas y las administraciones públicas están defendiendo los intereses de la ciudadanía de sus respectivos territorios ahí es donde debieran manifestarse libremente

digamos de diálogo y de negociación decía usted hay problemas de relación

de qué es lo mejor para cada territorio pero no hay que perder de vista nunca

estos fondos realmente suponen sin renunciar por supuesto a nuestras legítimas aspiraciones de desarrollo económico de euskadi como territorio como comunidad autónoma miren decía el señor consejero respondiendo al señor otero

un papel que no les corresponde no vamos a confundir planos el proyecto presupuestario incorpora un modelo de gestión suficiente transparencia garantía y flexibilidad informativa para que el aprovechamiento y maximización de los fondos tenga un seguimiento y un control parlamentario riguroso

le aplico la misma fórmula le aplico la misma fórmula

respecto a la gobernanza miren los diferentes

representan un marco de cogobernanza en el que se deberán consensuar esos criterios para la ejecución de los proyectos que se contengan en el plan de conformidad siempre porque así se ha hecho desde el primer minuto siempre

establecidos por la comisión europea en el reglamento europeo del mecanismo de recuperación y resiliencia sobre la participación de las autoridades locales y regionales se podrá mejorar seguramente ese sistema tendrá fallos se podrá mejorar pero de ahí a plantear como planteaba usted señor gordillo en su propuesta

me parece que es una falta de respeto al gobierno de españa sería una falta de respeto al gobierno vasco y a cualquier gobierno de una comunidad autónoma las administraciones públicas no incumplen

tragásemos por el tema de cumplir el reglamento de qué de qué creo que le he demostrado en mi intervención que el reglamento se está cumpliendo miren yo a veces sospecho

que ustedes señor gordillo su grupo quieren echar a veces

y en este caso está más claro que nunca usted y su grupo al que pertenece el partido popular se fueron a europa a

para que no tuviese la posibilidad de esos fondos europeos de acudir a ellos su grupo el partido popular lo hizo y la noticia de hoy es que hay un acuerdo entre el partido popular y el grupo populares europeos para exigir

que a ningún otro estado más controles a españa que en ningún otro estado están pensando de verdad ustedes en españa

de patriotas poniendo palos en las ruedas para que esto funcione poniendo ante semejante reto histórico para hacer frente a una pandemia van ustedes de verdad

diciendo que está incumpliendo dónde estamos dónde estamos y ya que ustedes se declaran autonomistas como decía el señor otero en fin cosas vieres querido sancho

y lo que nos queda y lo que nos queda bien yo quería finalizar muy brevemente señora presidenta es verdad que este plan el plan de recuperación transformación y resiliencia se va a desarrollar

y si no entendemos de verdad la complejidad y la necesidad de contar con el visto bueno de la comisión europea hasta para mover un papel no habremos entendido que aquí no solamente nos jugamos la recuperación económica de un estado de un país no solamente nos jugamos la recuperación económica de una comunidad autónoma

porque esto no va solo de recuperación económica pura y simple de países esto va de que estamos jugando a estrategia geoestrategia política y económica

a situaciones de invasiones como está pasando con china con estados unidos para hacer de verdad el continente europeo de hacerle frente a un reto que por primera vez se plantea que es la mutualización

eso va este reto si no lo entendemos no habremos entendido nada

que no es fácil gestionar la pandemia no ha sido fácil para nadie ni aquí ni en el resto del mundo todas nos hemos visto afectadas y menos fácil será si prima la desunión en lugar del encuentro

lamentablemente donde solo se encuentran cómodas es en el escenario de confrontación y crítica quizá porque no saben jugar otro papel porque no quieren asumir la parte de responsabilidad que les toca porque solo persiguen sacarnos del tablero pero eso no lo deciden ustedes

cada uno señor otero solicitan en su enmienda llevar a madrid una agenda vasca conjunta pues eso hoy es imposible

no quieren nada ni agua llevamos mucho tiempo defendiendo la agenda vasca en madrid y es la agenda no de este partido al que represento sino la agenda de los y las ciudadanas y esa agenda empieza aquí hay que jugar primero en casa

nunca vista hasta ahora pero resulta ciertamente complicado cuando eh bildu mantiene una intensa disputa contra el gobierno vasco y el partido nacionalista vasco eta

pero previamente acusan al gobierno de actuar en solitario de no contrastar con nadie y de favorecer a empresas amigas

estas teorías conspiranoicas porque este no es el camino al diálogo y al acuerdo que tanto

de contraste con todas las instituciones y agentes implicados de hecho se ha creado una viceconsejería específicamente para los fondos europeos una dirección hay una comisión interdepartamental un trabajo intenso con las diputaciones forales con eudel

por ejemplo hoy mismo por la tarde una reunión con el tercer sector social de euskadi sareen sarea

analizando los fondos europeos con usted señor otero y usted estuvo presente en dicha reunión en esa reunión explicativa y esto es cumplir el dieciocholauq

y sigo aquí en esta casa debates monográficos comparecencias preguntas en pleno las previsiones de comparecencias en la ley de presupuestos eta bai legea betez

y el del gobierno vasco es el del trabajo intenso y discreto de menos circos y más realismo

y pese a ello este gobierno lo analizó y les digo más de las veintiocho líneas ideas del citado documento entre las políticas públicas del gobierno vasco y euskadi next las contempla todas

que es lo que exige europa por tanto en esta dinámica y esquema de trabajo la petición de una oficina estratégica sinceramente creo que no aporta valor pero

han presentado en el congreso que es donde se está cocinando el plan una propuesta igual

no han presentado nada de esto me temo que eh bildu no tiene muy claro el papel del gobierno y el papel de los partidos

organizar informar a este parlamento decidir contrastar con el resto de instituciones y defender los proyectos ante el gobierno español y a los grupos nos toca preguntar impulsar iniciativas controlar y también presentar alternativas

ni gestionar ni diseñar ni ejecutar el gobierno ha hecho lo que le compete y eh bildu

por qué aquí no se ponen también del lado del gobierno y le apoyan en la defensa de los proyectos vascos parece que siempre es la misma pregunta

porque es el momento de aunar fuerzas por y para euskadi de quitarse complejos porque pactando con el pnv quien gana es euskadi

hori da bidea una vez más eh bildu se va de la mano con vox

sin lanzar un mensaje positivo de unión más aún cuando estamos tratando los tan ansiados fondos europeos y cuando el pasado nueve de mayo el día de europa y recordando la declaración de robert schuman se inauguró oficialmente la conferencia sobre el futuro de europa

no ha habido una oportunidad de reflexión como esta sobre qué europa queremos para el futuro

para hacer frente a la crisis la demagogia y los radicalismos por los que atraviesa el viejo continente

sino por lo contrario por más europa por una verdadera unión política fiscal y bancaria con más cesión de soberanía nacional a las instituciones comunes

una europa en la que euskadi sea un sujeto político en pie de igualdad con el resto de los actuales estados de la unión buscando una europa más social y más sostenible

bueno lo sorprendente de todo esto es que ya hayamos acabado de una interpelación que

figuraba en el texto transaccionado pues hayamos acabado hablando

a cuestiones que ya se desarrollan por parte del gobierno de coalición

poco logra más allá de un ejercicio de retórica y de discurso en cuanto a la crítica de lo que hace

que va a salir hoy adelante pues nada nada figura la verdad es que

resulta un poco sorprendente y que en fin haya hecho falta esto para que el pnv como se ha dicho en su intervención

si hubiese sido tan fácil desde luego lo hubiesemos hecho antes lo digo porque si hacemos un repaso a los meses anteriores lo que ha tenido que ver con la gestión de los fondos europeos o el plan estratégico que el gobierno vasco mandó finalmente al gobierno de españa la verdad es que

verano en los medios de comunicación después interpelación del señor otero posteriormente monográfico pero antes del monográfico una comparecencia del consejero fruto precisamente del monográfico si no llega a ser por eso igual ni siquiera hubiese habido una comparecencia y posteriormente sí una conversación

previamente de conocer los proyectos enviados al gobierno de españa una conversación privada es decir ese es básicamente el marco

por lo menos nuestro grupo en relación con esta cuestión en concreto en cualquier caso bienvenidos sean los buenos tiempos si es que esta iniciativa del partido popular ciudadanos a partir de ahora en esto que para nosotros y nosotras es estratégico pues bueno termina gestándose un puente de colaboración de diálogo porque desde luego nos vendrá bien en este país y también vendrá bien en lo que tiene que ver con el ejercicio

toda nuestra predisposición como he dicho en mi primera intervención para que en algo tan fundamental y que va a condicionar las vidas de todos nosotros para los próximos años podamos encontrar lugares de encuentro entre todas las formaciones políticas que aquí están representadas

esa invitación y ese ofrecimiento y que sea real y se materialice y que no acabe siendo

en otras ocasiones hemos escuchado por parte del gobierno vasco o de los grupos que lo sostienen eskerrik asko eskerrik asko soto jauna eztabaida amaituta

o no a la hora de gestionar los problemas y eso es algo

es comprensible que se puede entender y hasta aceptable pero lo que no es aceptable lo que es inaceptable es mentir como lo es utilizar la mayoría absoluta

esas mentiras y eso es lo que ha hecho la consejera de salud y eso es

en este caso los grupos que sostienen a este gobierno por eso pedimos que el parlamento repruebe su actuación

y no otro es el debate de fondo que tenemos si la mentira es o no un instrumento político aceptable para defender la gestión de un gobierno nosotras tenemos claro que no lo es que el gobierno siempre tiene que decir la verdad

aclarar investigar contrastar escuchar a todas las partes implicadas pero ante todas esas oportunidades que les hemos dado no han sido capaces de responder con sinceridad y honestidad no nos dijo la verdad nos mintió y podía haber dicho y además le he dicho

y lo hubiéramos entendido perfectamente si nos hubiera dicho por ejemplo

y teniendo las características que tiene que la vacunación debería de ser como en las residencias de mayores lo hubiéramos aceptado lo hubiéramos entendido y nos parecería mire hasta si nos hubiera dicho que era novata en el cargo que no conocía los criterios el proceder y que metió la pata hasta lo hubiéramos aceptado pero no nos mintió nos mintió con santa marina

por ejemplo justifican en una respuesta que llegó ayer sobre unas vacunaciones de santiago

más irregularidades tenemos en la vacunación en las direcciones de diferentes osi al inicio de la campaña por qué no han querido materializar

qué quieren ocultar la sociedad vasca se merece y debe de saber

a conocer toda la verdad y el pnv y el partido socialista

a la sociedad vasca por qué quieren imponer el relato único de la consejera qué quieren ocultar por qué no quieren que se oigan todas las voces de las partes implicadas

sea investigado a sí mismo con rigor y honestidad en vez de priorizar la verdad se han dedicado a poner el ventilador en marcha

y por último han terminado con eh bildu con unas declaraciones que tristemente lo único que emanaban era miedo y odio hacia eh bildu

asimismo que los responsables del departamento de salud y los de osakidetza

de enero cuando ha quedado demostrado que ya el quince de enero por lo menos el quince y además la directora de osakidetza lo da por bueno perfecto

también nos dijo la señora consejera puedo entender que les resulte más atractivo

guzti hau ez da nahikoa gaitzespena aurkezteko para terminar este primer punto decir que no nos merecemos esto no nos merecemos un gobierno que nos mienta que maneje las vacunas o todo lo que llega a sus manos como si fuesen de su propiedad

este país fuera suyo y este parlamento fuera su cortijo y además no asuman su responsabilidad herritarrak momentu honetan

guztiona la soberbia el no escuchar pues no es la mejor de las formas de las maneras de gobernar

tres veces ha dado por zanjado el partido nacionalista vasco este asunto de las vacunas irregulares que se realizaron al menos

y basurto el primero en darlo por zanjado prácticamente fue curiosamente

que la propia consejera o incluso que el propio lehendakari y hace unos días cuando conocíamos que esta iniciativa de reprobación llegaba al parlamento escuchábamos al grupo parlamentario del partido nacionalista vasco

de esta propuesta nosotros pensamos que estaba en su mano haberlo evitado

haber evitado que algunos grupos como el mío estuviera hoy en este planteamiento de reprobación porque es cierto que la iniciativa original de bildu estaba ahí desde hace meses que la podíamos haber discutido hace tiempo sobre todo cuando todos los grupos de la oposición ya planteamos en su día de una manera

debía de dejar el cargo como asunción de responsabilidad política de lo sucedido pero este es el motivo más que de sobra en nuestra opinión precisamente para que los grupos que apoyan al gobierno hubieran facilitado en todo este tiempo el ejercicio de la transparencia que este asunto demandaba

de escuchar todas las voces de las personas

implicadas en este desagradable asunto todos los grupos excepto aquellos dos en los que se sustenta el gobierno hemos pedido esto en uno u otro

planteamos la fórmula de la comisión de investigación pensábamos que era la más oportuna para poder escuchar todas las voces es cierto sé que me lo van a decir no fue

otros grupos plantearon y así lo solicitaron comparecencias de distintos protagonistas de este escándalo más allá de la fórmula concreta el asunto era lo suficientemente grave en mitad de una pandemia como esta como para haber estado a la altura y haber permitido

a los directores de los hospitales cesados a los responsables de salud pública y a quienes no cumplieron con la obligación de registrar las vacunas

de basurto cuando menos en el caso de mi grupo parlamentario dijimos desde el principio que el principal interesado en que se aclarase bien todo era el propio gobierno vasco para que tuviesen que asumir responsabilidades y así lo dijimos quien tuviera que hacerlo

la sospecha de la duda sobre quien no tuviera responsabilidad alguna pero la intencionalidad descarada del pnv y con él del partido socialista

distintos a la propia consejera en la comisión ha demostrado que el gobierno no quería transparencia sino pasar página lo más rápido posible aunque eso supusiese dejar muchas preguntas e incógnitas en el aire

con el argumento de que había otros asuntos previos a tratar en la comisión para finalmente apoyándose en la mayoría absoluta

la propuesta de no sustanciar esas comparecencias se ha cercenado en nuestra opinión descaradamente la posibilidad tan siquiera de escuchar de escuchar a quienes estaban en el centro de lo sucedido a algunos con responsabilidades ya demostradas

y otros con un papel fundamental a la hora de explicar lo sucedido sobre basurto era necesario escuchar a quienes decidieron no registrar las vacunas un acto de obligado cumplimiento del que la consejera no supo dar explicaciones hasta hace apenas unas semanas que nos trajo las conclusiones de una investigación que nosotros

unas explicaciones en absoluto convincentes así se lo trasladé a la propia consejera en la comisión

inoculadas al gerente y jefes de servicio y la cosa no se aclara

y entonces ordena el registro y ahí no hay ningún problema para registrar

decir que no es necesario conocer más y escuchar a quienes estaban en estas vacunaciones desde luego era necesario escuchar a los protagonistas entre ellos también a la dirección de salud pública que envió a santa marina vacunas suficientes para vacunar a todo el personal

elkarrekin podemos izquierda unida planteó la necesidad de que la consejera se hiciera a un lado cuando conocimos los famosos mensajes que había intercambiado el director del hospital santa marina con la propia consejera con la directora

porque ahí podíamos comprobar que la versión que se nos había dado hasta el momento

a lo que allí se decía pero también planteamos la necesidad de contrastar bien todas las informaciones

de todos los protagonistas porque a pesar de que para algunos entre ellos mi grupo esos mensajes demostraban que la consejera era consciente de que se vacunaba a todo el hospital ella el gobierno vasco y los grupos que sustentan al gobierno vasco entendían que no era así

ella no entiende que se trate de todo el hospital ya lo explicó para otros estaba claro el propio director del hospital

cómo puede ser que no podamos contrastar una acusación tan grave en sede parlamentaria

para nosotros el tema parece evidente pero aclarémoslo tenemos que aclararlo

ustedes tienen su versión y el gobierno plantea hechos a nosotros esto nos parece un insulto al beneficio de la duda que mi grupo aun con la información que teníamos estaba otorgando a la consejera cuando planteamos bueno escuchemos al resto

de la propia consejera básicamente y ha sido por el bloqueo del gobierno entendemos por supuesto con el apoyo de los grupos que lo sustentan

nosotros pensamos que tan irresponsable sería por nuestra parte creer a pies juntillas lo explicado por quienes afirman que la consejera era plenamente conocedora de lo que estaba pasando

tan irresponsable sería esto como lo sería tener fe ciega en lo que nos cuenta el gobierno

en el parlamento sobre todo cuando hemos insistido en que nos parecen poco verosímiles

muy concretos de todo el asunto y cuando seguimos teniendo dudas sobre otros aspectos muy importantes y si finalmente no hemos tenido la posibilidad de escuchar al resto de personas y responsables implicados porque quienes apoyan al gobierno lo han bloqueado y han hecho todo lo posible para que no les escuchemos para nosotros imposible que le demos un voto de confianza hoy a la consejera ante esta propuesta de reprobación por mucho que no sea en nuestra opinión la guerra principal porque ya lo he dicho en comisión más de una vez no ganamos nada nuestro grupo con que la consejera salga o no salga porque ni la reprobación ni la dimisión que nosotros en su día ya pedimos

lo que tenemos que escuchar del resto de responsables pero esa maniobra de los grupos del gobierno

que nos lleva a tomar una posición claramente a favor de la reprobación de la consejera que hoy se nos presenta si bien para nosotros lo fundamental lo diré una vez más es lo que planteamos en nuestra enmienda que se depuren todas las responsabilidades que se tengan que depurar tanto en lo relacionado con el suministro de vacunas descontrolado en santa marina

en basurto pero esto es imposible si no se nos permite a los grupos parlamentarios como así ha pasado indagar con mayor profundidad en lo sucedido cosa que han evitado el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi por lo tanto nosotros vamos a mantener

que sustancia lo fundamental del asunto para que no se vuelva a dar por zanjado por cuarta vez un asunto que no se debería dar por zanjado y vamos a apoyar también las propuestas de reprobación que hoy se presentan besterik ez

zuela el grupo que represento nunca pensó que llegaríamos a tramitar esta iniciativa a debatir esta iniciativa ciertamente no pensamos que usted señora consejera de salud a estas fechas seguiría

salud como máxima responsable estaba en su mano haber llegado hasta aquí

que usted iba a tomar la decisión voluntariamente de dejar su responsabilidad tras todos los acontecimientos sucedidos a lo largo de estos meses como consejera de salud del gobierno partido nacionalista partido socialista de euskadi

invitado a dejar su cargo acontecimientos que sin duda han puesto de manifiesto una actitud de huida hacia adelante de tapar el asunto de las vacunaciones irregularidades

e incluso demonizar a todo aquel que discrepaba de su opinión o de las tesis que usted propugnaba a lo largo de estos meses desde su visión no ha aceptado la más

usted rechazaba cualquier pregunta aclaración afirmación dato que se le preguntaba incluso los veía cómo ataques personales una actitud desde luego muy contraria señora consejera a lo que debe de ser el ejercicio de la actividad política en una democracia consolidada

pluralidad política legítimamente representada en este parlamento esa ha sido su actitud y no ha cambiado y oportunidades

una enmienda a la propuesta con varios puntos entre ellos la reprobación de la consejera de salud por varios motivos

por la pandemia en general por obstaculizar no colaborar faltar a la verdad en el episodio de las vacunaciones irregulares a continuación me voy a centrar

zerrendetan la deficiente gestión del proceso de vacunación lento desordenado caótico los primeros en la cola con listas cambiantes

setenta ochenta por ciento este no ha sido el criterio a la hora de mantener reservas estratégicas no ha existido un verdadero plan

los colectivos a priorizar dentro de los grupos esenciales

por la propia comisión nacional de salud pero es que las competencias en salud pública radican en las comunidades autónomas ordenar planificar un proceso de vacunación

ha repercutido en la ciudadanía problemas de pérdida de usuarios en la web episodios

centenarios desaparecidos personas citadas descitadas y posteriormente citadas personas mayores a las que se les cita a vacunarse a horas de la noche que son claramente incómodas personas que acuden a la citación y no contestan

personas que se vacunan porque ellas expresamente iban a su centro de salud o llaman por teléfono anuncios de nuevos colectivos a vacunar cuando no están finalizados los anteriores personas de alto riesgo que todavía no saben cuándo se van a vacunar en definitiva señora consejera el resultado de su gestión al frente del proceso de vacunación ha sido

mucho tiempo como le decía liderando el ranking pero por la cola las consecuencias una población desconcertada

y sucediendo eso se supone en una de las mejores sanidades de la comunidad de españa desde luego

y se ha acabado de caer con la gestión de todas estas cuestiones

episodio en el que no ha habido nunca ninguna voluntad de llegar hasta el final ni de ser aclarado por parte de usted señora consejera

ha tenido oportunidades usted se ha enredado en su verdad que no es la verdad y nos ha querido

y no ha sido así no ha querido depurar responsabilidades y ha faltado clamorosamente a la verdad de los hechos y usted lo sabe en cuanto a la vacunación de basurto

le hemos preguntado y por eso hemos solicitado las comparecencias de otras personas

en este tema porque tenemos dudas de si las vacunaciones

nos detalla no nos creemos señora consejera que nos diga que usted se entere de estas vacunaciones irregulares el día diecinueve por medio de un medio de comunicación no nos lo creemos pero ahí está su verdad contra

es miembro del labi jefa de la unidad básica de prevención de la osi de basurto supongamos que se vacuna el día quince

porque no quieren que se sepa la verdad porque quiere que solo se mantenga su verdad que es la mentira sobre este asunto por qué se vacuna cuando no es una profesional de primera línea

como los médicos de urgencias de basurto por qué esa fecha no se vacunaron otros responsables de las unidades de prevención del resto de las osi y justo además se vacuna al día siguiente que empieza el proceso de vacunación deberíamos de hablar del registro de todas estas vacunaciones porque no registrar en un acto médico

delictiva por las consecuencias que puede acarrear en relación al hospital de santa marina

y por qué porque el hospital de santa marina ya sé que me dice usted no es una residencia es un hospital sí es un hospital pero se asemeja a un centro residencial

se pretendía hacer con esa vacunación una burbuja social se autoriza en un momento además que usted nos detalla que en esa semana no llegaban viales

al hospital para vacunarse sin autorización debida y sin su conocimiento porque usted autorizó la vacunación de la totalidad de la plantilla

por eso los mensajes que le van enviando ese día corroboran cómo se suceden los acontecimientos por eso el director gerente se saca un vídeo

nadie que sepa que no se puede vacunar no se saca un vídeo y lo divulga por las redes de comunicación se llama incluso a un medio de comunicación se le informa detalladamente si alguien está

directora de osakidetza de cómo se va desarrollando el proceso de vacunación a lo largo de ese día y por cierto casos muy distintos el de basurto y santa marina que sistemáticamente usted ha tratado de equiparar y mezclarlo todo para

de la confusión o llevarnos a esa pretendida ceremonia de la confusión pero es que la mentira tiene las patas muy cortas señora consejera y algún día se sabrá la verdad usted no ha querido responder a muchas de las cuestiones que hemos planteado

que a día de hoy siguen sin respuesta por ello este grupo solicitó varias comparecencias para que se sustanciaran en la comisión de salud

dónde está el problema señora consejera señor lehendakari

en aras a la transparencia dónde está el problema si son el gobierno de la transparencia

y personas que puedan aportar información de interés en este parlamento la casa de todos los vascos donde estamos representados todos los vascos

no es acaso ese el interés de todos o debería de ser de interés de la propia consejera de este gobierno y del lehendakari y de los grupos que apoyan al gobierno

se mantenga solo su versión y que en la futura hemeroteca

no ha remitido y no nos dio el expediente informativo en relación a estas investigaciones que se lo requerimos en la propia comisión por qué tanta ocultación señora

por qué tanto miedo por qué miedo a saber la verdad y voy finalizando

a la labor que tenemos que desarrollar como parlamentarios y desde luego a poder saber la verdad

su ausencia de transparencia por no haber contribuido a esclarecer los episodios de las vacunaciones irregulares

sino todo lo contrario por faltar el respeto a este parlamento de forma reiterada y por faltar a la verdad de forma sostenida desde el principio

y por entender que no es digna de mantenerse

que está muy tocado hemos propuesto su reprobación porque creemos sinceramente que la sociedad vasca se merece saber la verdad queremos saber la verdad y no queremos que se mantenga más esta mentira en el tiempo amaitu y porque creo que nos merecemos y acabo señora presidenta un gobierno responsable

hemos presentado esta enmienda en la que en uno de los puntos se propone su reprobación besterik gabe

señora presidenta yo estoy absolutamente de acuerdo con que la ciudadanía merece conocer

a ello hoy por fin día trece de mayo vamos a tratar esta proposición no de ley de eh bildu en la que se pide la reprobación de la

hoy trece de mayo resulta que fue registrada hace tres meses y un día el doce de febrero

muy a las claras que eh bildu tenía emitida la sentencia de culpabilidad desde el inicio del procedimiento eh bildu

tiempo mientras que en las comisiones de salud hemos estado oyendo que la oposición quería que compareciera uno u otro

que por cierto nadie ha registrado nunca nunca

hacerse una investigación interna y gestiones posteriores lo cierto es que la oposición desde el veintisiete de enero tenía absolutamente clara la culpabilidad de la consejera pidiendo su dimisión y su cese

es que eh bildu registra el doce de febrero esta reprobación y estos son los datos sin esperar a ningún tipo de investigación sin esperar a que debatamos sobre la posibilidad de que comparezca alguien o no por cierto luego lo veremos

la mayoría de ellas presentadas después de que el veintisiete de enero pidieran la dimisión y que del doce de febrero registraran esta propuesta

que hoy discutimos esto es para que nos entiendan como si alguno de nosotros fuéramos

acusados a un tribunal y al entrar nos dijeran tome esa es su sentencia es culpable pero espere un momentito que le vamos a montar ahora el juicio

y por mucho que hoy nos quieran plantear otra cosa una realidad alternativa que es lo que he visto que han querido hacer lo cierto es que ustedes lo dejaron registrado y por escrito ese doce de febrero es decir esto que estamos diciendo esto que estoy diciendo

son hechos son hechos y esa es la diferencia que son hechos no es verdad que esta propuesta

sea consecuencia por tanto de que no les haya satisfecho de investigación no es verdad que esta propuesta de reprobación sea consecuencia de que las explicaciones de la consejera no les han parecido suficiente y mucho menos

a las comparecencias que ustedes han planteado es que ustedes tenían decidido que la consejera era culpable y no les importaba ni los resultados de ninguna investigación ni mucho menos las comparecencias y esto de las comparecencias me parece muy importante porque es que ahora

cinco pedidas después de la solicitud de dimisión y cese cuatro pedidas después de registrar la reprobación

después de haber sentenciado la culpabilidad de la consejera de verdad nos quieren hacer creer que las comparecencias para ustedes eran absolutamente necesarias para dirimir las responsabilidades de todo esto no es creíble y lo vuelvo a decir no son conjeturas son hechos por lo tanto hoy no estamos aquí porque no les hayan convencido las explicaciones que se han dado hoy no estamos aquí porque no crean suficiente la investigación y mucho menos estamos aquí porque no hayamos accedido a las comparecencias hoy estamos aquí trece de mayo porque en enero decidieron que la consejera era culpable y el doce de febrero

porque para ustedes había una culpabilidad con independencia de investigación con independencia de explicaciones y con independencia de las comparecencias

esa es una actitud absolutamente inasumible miren desde el principio los socialistas lo dijimos claramente

nunca debieran haber sucedido los protocolos sobre quiénes eran las personas destinatarias de las vacunas eran claros y estrictos y el objetivo era en aquel momento

más vulnerables o a los más expuestos al riesgo eso debía respetarse siempre y sin ninguna excusa y por eso nos pareció bien que desde el departamento se adoptará la decisión de apartar de sus cargos

nosotros siempre hemos trasladado la misma postura respecto a los hechos que fuimos conociendo y sobre los que se nos ha informado en la comisión en varias ocasiones cuatro si contamos la comparecencia ordinaria en la que nos informó inicialmente la propia consejera de la dimisión y el cese de los dos miembros del personal

en las instrucciones dadas por el departamento para la priorización de las personas a vacunar nunca estuvo contemplado como tal el personal directivo

quienes lo hicieron lo hicieron saltándose la priorización hecha por el departamento y así lo sintió el propio departamento porque lo que hizo fue apartar inmediatamente de sus cargos mediante cese y renuncia a los dos responsables

sería importante recordar en qué momento se hizo porque

pasaban en otras comunidades autónomas por cierto donde gobiernan partidos que hoy piden el cese de la consejera y allí sus responsables políticos en vez de cesar a estas personas lo que hacían era apuntalarles en el cargo hasta que los medios de comunicación los tiraban abajo y eso

y por cierto hay que recordar que el día veinte de enero es la propia consejera como he dicho

tanto de los hechos como de la decisión de apartar de sus cargos a estos responsables fíjense además me parece

dicen que no han podido conocer los hechos pero yo he venido aquí a hacer un relato mimético de los hechos

el veintisiete de enero y si no conocen los hechos

yo creo que no es asumible y en esa misma fecha el veinte de enero nos informó de que se iba a proceder a la recopilación de información y comprobación en otros centros llegando a las conclusiones que el veintisiete de enero y el diez de febrero nos trasladó en sus comparecencias

que se plantearon en esas comparecencias y también hemos sabido que la propia consejera elevó incluso una consulta a la comisión

con el resultado que todos conocemos por tanto hay una primera conclusión que no perder de vista e insisto desde el propio veinte de enero el departamento ya adoptó el inicio de medidas para esclarecer los hechos

habían renunciado y cesado respectivamente y a los socialistas esa reclamación de responsabilidad nos parecía y nos parece

por la exigencia de ejemplaridad por cierto exigencia que se volvió a materializar cuando de forma inaceptable un alto cargo entendió que podría salir de su municipio para jugar al golf

evidentemente no pero es que eso lo asumió el propio departamento desde el principio es que ya el veintisiete de enero la propia consejera nos decía y leo el diario de sesiones

desde uno y otro lado estábamos hablando de cosas diferentes desde el primer momento nosotros

se derivaba que había evidentes puntos de mejora e incluso de crítica y le pedimos a la sailburu que se adoptaran medidas para evitar que pudieran repetirse que creemos que es lo importante que creemos que es lo que preocupa y ocupa a la ciudadanía y lo cierto es que en la propia comisión la consejera lo asumió y nos dio cuenta de esas medidas que se estaban adoptando

es que han dado fruto porque no se han repetido yo creo que en el interés de todos los representantes debiera estar que la sanidad vasca

como esta de pandemia global la obligación de los responsables del departamento es garantizar que las cosas se hagan bien y trasladar un mensaje de confianza en el proceso de vacunación y nos consta que el departamento está empeñado en esa doble tarea poniendo todos los medios a su alcance corrigiendo las deficiencias que claro nos encontramos y se corrigen y articulando mecanismos para llegar a los hitos

marcado desde aquí y que se han marcado también por el gobierno de españa que por cierto es a lo que estamos que es lo que de verdad preocupa a la ciudadanía y como dije la semana pasada frente a quienes han querido hacer de agoreros durante estos últimos meses frente a los que se han instalado en el todo mal y todo vale

con datos de ayer en euskadi tenemos un cuarenta coma nueve por ciento de la población vacunada con al menos una dosis y un diecisiete por ciento con la pauta completa

pero por lo que parece quienes avalan hoy esta reprobación entienden que ese éxito que es colectivo debe ser tal y como dicen en sus iniciativas fruto del descontrol

les aviso que vamos a votar que no a las proposiciones

el diecinueve de enero por la tarde del departamento de salud recibe una llamada por la que comunican

el departamento indaga y confirma que el director de basurto y otro personal sanitario habían utilizado sobrantes de vacunas al tiempo descubrieron que tales vacunas no se habían registrado y abren expediente informativo en esa indagación

se había vacunado todo el personal incluido el gerente tres liberados sindicales el personal del bar

el día veinte la consejera lo explica en comisión y concluye que un gerente había dimitido

se habían depurado responsabilidades en veinticuatro horas y a pesar de todo la oposición levantó la voz y se hizo la escandalizada

incluso que dijera que era una novatada que estaba aprendiendo pero hombre si el primer día que vino la directora de osakidetza que se estrenaba esa sí que era novata

le dijeron antes de empezar a preguntarles nada que no debería de estar sentada en ese sitio

generosamente la novatada de nadie me imagino

de lo que era este parlamento el gerente de santa marina ofreció una entrevista y desveló unos mensajes privados que por cierto también nos mostró la consejera independientemente

ustedes reaccionan dando por buenas las explicaciones

y acusan a la consejera de mentir a la ciudadanía ni más ni menos

que el gerente de santa marina no duda en aprovecharse de su filiación

ningún grupo de la oposición tuvo el menor gesto de agradecimiento por la consejera por haber destapado y explicado el hecho cuando podría haberse dado por enterada del caso

altas tasas de covid lo que es cierto y que todos deberían vacunarse incluidos el gerente y los liberados sindicales nadie

es lo que usted ha dicho señora ubera que podía haber dicho eso pero decir eso era mentir eso era mentir no lo hizo así porque había un protocolo que hablaba de vacunar al cincuenta por ciento y no a los gerentes y el departamento descubrió que habían vacunado a todos sí

a la hora de enviar más viales de los necesarios eso es mentir o es decir la verdad en un momento en que se empezaron a poner vacunas

o todo el personal no están pensando en la totalidad del personal sino en todos los que debían vacunarse no son capaces de abstraerse

yo no solo le creo estoy convencido de que dijo la verdad porque además contarla le resultaba más complejo

y desde que confirman que se hizo el día quince particularmente la señora garrido

se vacunó o no o no le correspondía el quince o sí

y si para ello durante unos días se mantiene una mentira no importa

o decir falsas verdades para intentar soportar que la consejera mintió y qué me dicen del sistema que han utilizado

que cuando el jueves pasado la presentó la portavoz dijo que le habían presentado ese día

para luego en un giro semántico llamarle activar una proposición qué es eso

una comisión de investigación la presentaron sentenciando sin juicio con la reprobación de la señora consejera porque y cito textual había perdido toda la credibilidad para liderar la emergencia sanitaria y había quedado inhabilitado

que han estado actuando todo el tiempo con prudencia el doce de febrero ya le dijo esto a la consejera por escrito registrado por favor la prudencia

activarlo o simplemente era que habían sentenciado ustedes en febrero a la espera de ejecutar la sentencia en cualquier momento de interés para su estrategia política

y ya si eso a ver si encontramos algo y es que nada ha cambiado desde entonces salvo que la consejera explicó y resumió las conclusiones del expediente abierto en basurto

conjuntamente con el grupo socialista y fuimos nosotros nosotros no la consejera ni el gobierno los que pedimos que no se sustanciaran las comparecencias solicitadas al alimón por pp ciudadanos bildu y vox

que llevan desde el comienzo de la legislatura trabajando en la comisión de salud como compañeros de dormitorio

nuestra solicitud y retirada estaba suficientemente motivada y así se explicó en la comisión pues una vez explicado el expediente conocíamos de una manera definitiva lo ocurrido y seguir dando vueltas al molino no aportaba nada y menos traer a comisión a una serie de funcionarios del departamento de salud que esas eran las personas reclamadas

y como todos saben en los gobiernos se actúa bajo el principio de dependencia jerárquica

responder por las actuaciones de las personas que integran su equipo a ella le corresponde informar nombrar y cesar a las personas que forman su equipo la consejera ha sustituido a quienes cometieron irregularidades y la consejera ha concluido un expediente que nos lo explicó tema pues ella hablo en nombre de todo su departamento por cierto

todo lo demás ustedes lo saben es revolver embarrar aunque el suelo esté seco

que es lo único que saben hacer no lo vamos a permitir ustedes han activado

las ha tomado el grupo parlamentario luego la activación es para reprobar al grupo parlamentario lo otro

y ver venir a ver si nos viene bien para ejecutar la sentencia en primavera o no será que cuando usted señora ubera presentó la reprobación se encontró con que solo lo iban a apoyar pp ciudadanos y vox el trío de colón

no salir con ellos que van todo el día juntos que se le viera con ellos

y es que no era fácil su apoyo cuando usted no se lo quiso dar para crear una comisión de investigación hasta la señora eba blanco

y no la pidió porque ustedes sin más sentenciaron decidieron no apoyar la comisión de investigación

para luego después de sentenciar ponerse otra vez de acuerdo con vox pp y ciudadanos para solicitar a poquitos

esa comisión sin parecer que lo hacían cuando ya no tenía sentido

por eso votaremos no a la reprobación y votaremos sí a la continuidad de la consejera y de todo su gobierno

que están superando las enormes dificultades que supone gestionar en primera línea esta pandemia reprobar es legítimo hacerlo pero pierde toda su legitimidad

para extender sospechas infundadas y mentir señora ubera

con el que no firma transacciones pero con el que concierta permanentemente su activación y he dicho mentir porque mentir es decir que la consejera sabía lo que se estaba haciendo en santa marina mentir es decir que un médico de basurto se vacunó el día tres y mentir

vamos a votar que no porque la propuesta de reprobación es un juicio sumarísimo sin siquiera esperar a las explicaciones de la consejera sentenciaron el doce de febrero

nuestro voto va a ser no porque en la actual pandemia y ante la complejidad del trabajo que la administración sanitaria tiene que hacer

ustedes han decidido continuar con el griterío cuando la sociedad realmente pide calma y certezas

cuando la ciudadanía pide confianza y nosotros se la queremos dar votamos que no porque no se ha dado desde el departamento de salud ninguna actitud que pudiera pensarse genere desconfianza o duda y con eso

que se la inventarán porque esa es una de las formas de su ruin e indigente modo de hacer política

vuelcan todos los esfuerzos en intentar desmoronar su trabajo emborronar sus esfuerzos y deslegitimar su papel pero no lo han conseguido ni lo conseguirán

y de la que usted señora garrido dijo que cada vez valora peor su trabajo resulta que valora el trabajo sanitario del gobierno vasco en siete coma seis sobre diez y para que no haya dudas porque esto me lo dijeron que se había hecho en un batzoki en el último estudio de la federación de asociaciones

en españa euskadi aparece en primer lugar con noventa y ocho puntos cuando la de menor puntuación tiene sesenta y la media es de ochenta y por eso

nuestro apoyo al gobierno para que se vea que hoy el parlamento por mayoría

que a ustedes se les cuelen los suyos y encima traten de ocultarlo y totalmente inaudito y miserable que utilicen la mayoría absoluta

para vetar comparecencias para saber la verdad para dar cuentas a la sociedad eso sí que es miserable

esto no son unos tribunales y desde luego mi grupo ni con su enmienda

que hay pretende juzgar a nadie ni declarar culpable

a la consejera estamos hablando de responsabilidades políticas por actos en el ejercicio de una función

el día que en prensa aparece la información del director del hospital de santa marina que es un alto cargo de la administración pública

en la que es evidente que la consejera tenía conocimiento de que se vacunaba a todo el hospital cuando no era lo que se debía

entendimos y así lo dijimos públicamente efectivamente que procedía que la consejera creo que la expresión que utilizamos fue debía

políticas no es ninguna sentencia aun así como he dicho en mi primera intervención

pedimos y así lo dijimos en la comisión vamos a escuchar todas las voces porque aquí hay dos versiones diferentes de esa interpretación

se nos negó tan siquiera la posibilidad de esto porque se nos negaba

se nos dijo que lo del gobierno eran hechos y lo que estaba diciendo aquel director de un hospital un alto cargo de la administración

y nosotros por eso pensábamos que era importante conocer

y el principal argumento que han utilizado los grupos que sostienen al gobierno ha sido que la sentencia ya estaba marcada porque hubo un registro el doce o el trece de febrero de esa reprobación me gustaría saber qué nos dicen también

a los que hemos estado pidiendo que se conozca todo y que las y los parlamentarios podamos conocer todo podamos indagar

porque nos gustaría saber qué dicen los responsables de salud pública no que la consejera nos cuente

queremos saber qué dicen las personas que estaban en las vacunaciones irregulares de basurto y muy concretamente sobre el no registro de esas vacunaciones

no ha quedado para nada aclarada para nada aclarada

para nada y la cuestión por la que mi grupo

esta propuesta de reprobación y también la enmienda del partido popular no tiene nada que ver con las motivaciones que puedan tener uno u otro grupo para traer

su valoración de por qué las traen o no yo no voy a entrar en eso para mí está claro que en estos momentos con la actitud que ha tenido el gobierno ante este asunto

en este asunto solo se puede aprobar esas iniciativas de reprobación porque vuelvo a lo que dije al inicio de mi primera intervención creo sinceramente que hubiera estado

del gobierno a través de los grupos que sustentan al gobierno porque no nos engañemos

hubiera estado en su mano que hubiera un ejercicio de transparencia real sobre este asunto

y si ustedes están convencidos de su versión porque sí hay versiones aunque se nos haya negado

eso hubiera podido permitir que nadie hoy pudiera haber venido aquí a pedir la reprobación de la consejera si eso hubiera sido así

debate estoy convencido si eso hubiera sido así pero no lo sabemos y no lo vamos a saber porque ustedes hoy dan por zanjado por cuarta vez este asunto que veremos
si queda zanjado o no eskerrik asko hernández jauna

consejeros pero si la sentencia la ha dictado usted en un procedimiento judicial que es que no ha habido proceso judicial

con la mínima garantía seguridad jurídica al derecho de tutela judicial efectiva pero qué me están diciendo si ustedes han obstaculizado

a su versión lo que pudiera no corroborar dudas a su versión dónde está el problema en que comparezca el director gerente del hospital de basurto

la directora de salud pública el director médico de santa marina

la miembro del labi miembros de la dirección de enfermería del hospital de basurto de la subdirección de enfermería pero dónde está el problema

salvo que puedan decir cosas que a este gobierno no le gusten y que contradigan la versión

y ya finalmente también el lehendakari que corroboró y apoyó a la consejera es que no hay otra dónde está el problema en el gobierno que se erige

como el gobierno de las personas en que comparezcan personas en el parlamento vasco

un asunto turbio un asunto sobre el que persisten muchas dudas pero dónde está el problema

dónde está el buen gobierno dónde está el gobierno de las personas cuando no dejan venir personas a comparecer a este parlamento

unos hechos que yo creo que el primer interesado que tenía que estar en aclararlos es este gobierno

aquí lo que no se quiere es que se sepa la verdad o que se sepa una verdad distinta

vamos a ver otras versiones y con otras versiones podremos construir la verdad pero no podremos construir la verdad solo con la versión de la consejera

solo de parte claro ustedes tendrán la mayoría absoluta hoy suficiente para dar por zanjado este asunto

absolutamente de malas formas yo creo que el parlamento queda absolutamente tocado pero desde luego la mayoría absoluta

de salud ni la asunción de la mínima responsabilidad no tapa el que no se haya dicho la verdad

que no salga una reprobación pero otras cosas desde luego no va a tapar y dos cuestiones concretas

no es que creamos la versión del señor si yo no he hablado con el señor sabas o sea no tenido ni oportunidad por eso quería que viniera al parlamento la casa donde estamos representados todos los vascos

explicaran al grupo popular a todos lo que pasó en el hospital de santa marina pero no se nos ha dejado

pero me gustaría conocer su versión en aras a la transparencia en aras a legitimar la democracia consolidada que se supone que es la sociedad vasca y que tiene voz en este parlamento

porque parece ser que el problema solo lo ven los grupos que apoyan al gobierno en relación a la vacunación de la señora collazos

dice este gobierno le correspondía era personal de primera línea oye que nos explique cómo le fue la vacunación que nos explique que como se vacunó el día quince era personal de primera línea

es que no no no aclaramos entender sí entendemos

no la hemos creído y la vamos a seguir sin creer entonces usted ya tiene

de cara a los grupos de oposición en este parlamento yo creo que lo tiene ya

que ha visto cómo ha gestionado todos los procesos lo que tiene que ver con la gestión de esta pandemia el proceso de vacunación que ha sido caótico desastroso con criterios cambiantes la población desconcertada no hay más que salir a la calle con tasas duplicadas respecto a la media nacional con las medidas más restrictivas eso sí todo el día echando balones fuera culpabilizando a la ciudadanía

han sido incapaces de hacer un análisis epidemiológico serio para descubrir dónde estamos los contagios

si nosotros estamos a favor de medidas y de una desescalada ordenada pero medidas efectivas pero si es que ustedes mismos no saben dónde están las medidas efectivas viendo el número de contagios

merecemos gobiernos transparentes dignos que desde luego no obstaculicen investigaciones

y gobiernos que den la talla de verdad y gobiernos que no falten a la verdad y por eso

reprobamos hoy en este pleno su actuación señora consejera

nos reprobaron a nosotros unos cuantos ministros catalá montoro dastis incluso
una moción de censura y nos tuvimos que ir del gobierno por del partido nacionalista vasco eskerrik asko

recuerdan por qué verdad pues señora ubera ha elegido al mejor

porque el partido popular sabe perfectamente de estas cosas de las cuestiones en diferido y lo que hemos vivido hoy aquí es eso

en el que han venido ustedes a decir que no les hemos dejado investigar que no conocen los hechos pero cualquiera que haya estado viendo el pleno ha visto cómo han hecho un relato de hechos el mismo relato de hechos que la consejera hizo en la comisión

pero si están leyendo miméticamente lo que se entregó en la comisión nos dicen que

no han permitido ustedes que haya una investigación de que no nos han convencido las explicaciones de que han impedido que

veintisiete de enero la oposición la oposición también podemos señor hernández pide la dimisión de la consejera

doce de febrero la solicitud de reprobación en diferido que hoy estamos tratando

el señor iturgaiz porque yo he sido bueno en la primera pero señora garrido es que ni siquiera esperan al veintisiete

sagardui debe dimitir veintidós de enero veintidós de enero

no había nada más que una comparecencia de la consejera diciendo

y había dimitido uno de los altos cargos es que esa es la realidad

de doce comparecencias que han solicitado de doce nueve son posteriores a haber solicitado la dimisión y cese de la consejera

nueve de doce por cierto todas las del pp por cierto todas las del pp entonces yo lo que creo es que

miramos a la ciudadanía que nos ha puesto aquí lo que nos piden es que tengamos una cierta coherencia por supuesto

pero es que desde el día veinte de enero esas responsabilidades fueron puestas encima de la mesa con el cese y la renuncia de los dos responsables y lo vuelvo a repetir señora garrido que sale aquí a pecho descubierto pero esto no ha pasado en comunidades autónomas donde ustedes gobernaban

fueron vacunados irregularmente me estoy refiriendo a murcia y fue el propio consejero el que se vacunó

luego los medios de comunicación acabaron haciendo su trabajo y la presión no la pudieron contener

pero es que desde el día veinte cuando estábamos en esa comparecencia

y estaba yo la consejera nos dijo hechos cese y renuncia veinte de enero

ha comparecido ustedes han repetido muchísimas veces muchas frases que los medios de comunicación han recogido es que esto es lo bueno

lo han dicho aquí los ciudadanos y ciudadanas han llegado a oír que es que

lo han oído en múltiples ocasiones y los ciudadanos tienen que saber que esa comisión de investigación

jamás ha sido pedida en este parlamento porque ningún grupo de la oposición la ha registrado

hacer una semicomisión de investigación con unas comparecencias que plantean después de haber registrado la iniciativa que hoy debatimos para reprobar a la consejera yo creo que ese no es el camino miren

que el departamento explicó y que además tomó las medidas más garantistas que es apartar de sus cargos a esos altos cargos

a partir de ahí se han tomado las medidas oportunas para que esos hechos no se puedan repetir

hoy con nosotros está volcado en lo que preocupa de verdad a la ciudadanía que es el proceso de vacunación lo dije la semana pasada y con esto acabo señora presidente

al todo vale a esto no funciona estamos cumpliendo con los hitos a pesar de ustedes estamos cumpliendo con los hitos de vacunación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

usted ha reconocido que presentaron en febrero la reprobación y la activaron en mayo por ver si en ese tiempo tenían razón o no en la acusación de mentir

a ver si eso miren desde el doce de julio del año pasado en que perdieron las elecciones ustedes

y no han aceptado perder y se han dedicado desde el primer momento

y particularmente la pandemia todo lo que era pandemia leña las mascarillas

todo ha sido permanentemente así y además han encontrado permanentemente la solidaridad del grupo pp ciudadanos el noventa y cinco por ciento de las mociones

están pactadas con ellos de vez en cuando alguien hacía porque como al pp le da cosita firmar con ustedes las transacciones hacía de celestino para incorporar las aportaciones en las enmiendas del pp para que así lo votaran todos juntos eso ha sido un día y el otro

de la comisión de investigación que se estaba investigando por cierto

pp o podemos evitan comparecencias

verán la lista que les sale es decir que es algo

permanentemente utilizando datos falsarios la estadística es una conformación de las matemáticas que en principio es exacta pero

las subjetivizamos y no vemos el contexto es enormemente mentirosa y ustedes

no de una semana de la campaña número de pruebas

personas contagiadas en toda la pandemia euskadi cinco coma nueve por ciento españa siete

euskadi seiscientos uno españa setecientos cuatro ingresos uci desde el inicio por cien mil euskadi cincuenta y uno coma dos españa sesenta coma tres

euskadi catorce coma cinco por ciento españa trece esta cambia cada día vacunas al menos una dosis

un compañero suyo dijo que euskadi no es el que tiene más mortalidad de españa ni de europa del mundo del mundo y se quedó tan ancho es muy difícil saber los fallecimientos por covid porque si es con covid por covid es muy complejo la única manera e intentar calcularlo es ver la diferencia de fallecimientos en una temporada y en otra similares e intentar imputar como la única variable que cambia es la pandemia intentar imputar un porcentaje elevado de ese ascenso

y luego del nueve de marzo del dos mil veinte al veinticinco de abril del veintiuno

en españa un diecinueve coma dos siendo la menor dos coma uno canarias y la mayor

estos son los datos a partir de ahí yo me puedo preguntar y a qué viene

y la alianza con pp ciudadanos hasta que he caído

pero que también han visto que la oposición en madrid que hace el partido popular

al gobierno gobernar y es permanentemente dar leña y a ustedes pues se les ha ido un poco la olla y han traído el modelo y lo han importado aquí porque tienen al final son el mismo modelo

babesteko y yo fíjese que hasta ustedes se han dado cuenta de eso que han llevado para el jueves que viene

que han sacado del pleistoceno que la han activado porque saben que el pp está en contra y no tiene nada que ver con la pandemia para lanzar el nuevo mensaje

es exactamente eso lo que han sacado para el jueves que viene bien si esta es su táctica si esta es su táctica

en la comisión desagradables yo les animo a seguirla

y estoy especialmente agradecida porque creo que el acuerdo es fruto de que la situación de la comarca nos preocupa de verdad y de que todos los grupos reconocemos que no es tan idílica como en ocasiones se quiere aparentar hablamos de una comarca con un paisaje candidato a ser declarado patrimonio de la humanidad por la unesco con calidad y fama de sus vinos reconocidos a nivel nacional e internacional

pero lo décimos hacía dos semanas y volvemos a repetirlo de nuevo hoy toda esta imagen se contradice con la realidad de los pueblos que se vacían de las pequeñas y medianas bodegas y las personas viticultores que año tras año cesan su actividad para siempre a falta de relevo o a falta de un futuro digno

pero las cuatro más grandes las que más volumen de uva gestionan están pagando

diez empresas del sector que más facturan en españa la segunda

estos últimos cinco años ha pagado la uva blanca a menos de cero coma cincuenta euros el kilo y la tinta por debajo de cero coma sesenta otra de las grandes

no se la va a comprar esto es un despido en toda regla

se ha pagado por el ministerio a través del gobierno vasco a sesenta y cinco céntimos el kilo más de lo que han pagado algunas bodegas por el kilo de uva parece que a veces sale más rentable dejar la uva sin recoger que entregarla sin saber a qué precio te la van a pagar

un insulto a la dedicación y al trabajo de estas personas un menoscabo de su dignidad así no es de extrañar que las viñas que estaban hasta ahora en manos de personas agricultoras estén pasando

cómo es posible que con las ingentes cantidades de dinero que están cobrando no sean capaces de pagar unos precios justos y dignos a las personas

y diría más cómo desde la administración sabiendo que esto sucede no se toman cartas en el asunto y se deja fuera de las convocatorias a las bodegas que no cumplan con la ley de la cadena alimentaria

con la seguridad social por ejemplo se quedan fuera de las convocatorias de las subvenciones por qué no pasa lo mismo con aquellas que aprovechándose de su posición de dominio en el mercado arruinan y estrangula en el futuro de las personas que trabajan en el primer sector nik dakidala

puntuazio handiagoa dirulaguntzak banatzeko también en esta ocasión hemos intentado conseguir un acuerdo lo más amplio posible

conseguidos en otras instituciones es verdad que con esta propuesta cedíamos bastante terreno pero también creemos que la transaccional a la que hemos llegado supone un avance en el compromiso de conseguir precios dignos y justos para la uva instamos al gobierno a aumentar los controles de la dirección

y que se les pague la uva por encima de los costes de producción no hemos llegado a la meta pero es un buen comienzo además el hecho de que

supone un avance importante para la rentabilidad no solo de los vitivinicultores sino también de las pequeñas bodegas y bodegas familiares que en su mayoría

incentivar esa práctica nos parece una aportación fundamental por último la implicación del gobierno vasco y diputación foral de álava en el asesoramiento formación y ayuda a las personas viticultores para que sus rendimientos económicos sociales y medioambientales mejoren es imprescindible también para la viabilidad del sector tapia sailburuak

hoy hemos visto en la prensa las conclusiones de un estudio realizado por la consejería de agricultura de la rioja aprovechamos la oportunidad para animar al gobierno a que haga algo similar aquí estaría muy bien

en el informe se dice que los precios medios percibidos están ligeramente por debajo de estos costes ligeramente

son precios oficiales con facturas que los demuestran

cómo es posible pues es posible porque en la mayoría de los contratos se incorporan cláusulas en las que el viticultor que entrega las uvas dice que lo hace por encima de sus costes como se suele decir hecha la ley hecha la trampa tienen los viticultores otra opción sí por supuesto que sí defender su dignidad y no entregar las uvas a estos precios

sin recoger de la viña es esa una opción debemos evitar que los precios se fijen desde posiciones de dominio de algunas bodegas más aún cuando no cumplen con lo que establece la ley se está perdiendo valor en el primer eslabón del sector vitivinícola y no debemos consentirlo y esto no es algo nuevo

se da también en otras producciones de materias primas como la remolacha patata cereal

ganado de carne etcétera no nos cansaremos de decir que la supervivencia del sector depende del equilibrio entre las diferentes piezas que componen el engranaje

que cuidan con dedicación la viña quienes transforman la uva para producir vinos de calidad y quienes los comercializan en los distintos mercados

inviable económica y socialmente el futuro de uno de los agentes fundamentales del sector y de la propia comarca

para que se ponga de una vez en valor su trabajo y la calidad de su uva

y que podemos ezker anitza va a apoyar les agradezco hoy también su disposición e interés para negociar

no ha sido posible llegar a un acuerdo pleno con el grupo pp ciudadanos

porque el acuerdo es bueno tiene contenido como nos pedía hace dos semanas el señor barrio en cualquier caso

dejemos de mirar hacia otro lado dejemos de adornar la realidad y de camuflar la injusticia y pongámonos las pilas eskerrik asko eskerrik asko etxebarria andrea

sí muchas gracias señora presidenta señorías buenos días bien efectivamente en pocas semanas

de la rioja alavesa y del vino y de entender que el sector vitivinícola ha sufrido una crisis muy importante y necesita

es animar al sector animar a los agricultores a las personas que trabajan

y bueno y también animar a la administración a las administraciones a las distintas administraciones a que sean sensibles a que apliquen esas ayudas de las que hemos hablado y que se pongan de manifiesto

arreglar los problemas y este debate ya se ha tenido este debate ya se ha tenido recientemente

en las juntas generales de álava este debate prácticamente idéntico porque en relación a lo que se hablaba yo cuando la señora etxebarria estaba hablando estaba recordando incluso las palabras de mi compañero lópez de foronda hablando de esas mismas cosas de la uva verde en verde que se

del sector de que además de la uva y del vino hay que hablar de la remolacha o de otras cosas o de la patata y en ese sentido pues he visto que es

incidir o profundizar un poco más seis meses después aquí de lo que ya se identificaba como una grave situación seis meses en las juntas generales con ese acuerdo nosotros por eso pretendemos en nuestra enmienda de totalidad en el primer punto el punto dos

nosotros sí que queríamos reproducir lo que en

se dijo y que lo recuerdo porque en las juntas generales de álava

a la diputación foral de álava a que en el plazo de cuatro meses realizase

costes del cultivo de rioja alavesa en una explotación de tipo medio en los modelos productivos de vaso y espaldera

seis meses después aquí había cuatro la diputación no ha hecho este estudio

sí que ha hecho los estudios pertinentes en relación con la situación no pero la diputación foral de álava no lo ha hecho ni el gobierno vasco tampoco pero la diputación foral de álava no ha hecho una cosa que se le encargó

una muestra también de querer conocer el problema de querer de saber cómo hay que ayudar y de identificar los problemas

en su página web pero la diputación foral de álava ha incumplido un mandato y en ese sentido

un buen elemento que también podríamos haber trasladado al gobierno vasco en relación con

con solicitarle toda esa información en aquel acuerdo que nosotros queríamos trasladar como acuerdo las juntas generales de álava instaban a lo que hay que instar a la agencia

al control de los derechos y obligaciones establecidos en la ley de cadena alimentaria instruyendo o iniciando el procedimiento sancionador incrementando las inspecciones de oficio en colaboración con las comunidades autónomas con la vasca no y con las organizaciones profesionales

la dirección de la que se habla en la enmienda de transacción sí tiene valor pero

y supervisa toda esa cuestión y por eso estaba bien estaba mejor

la enmienda de transacción identificaba mucho mejor este tema aica no está transferida

esas cuestiones el tercer punto de las juntas generales instaban

a la transformación comercialización tenga en cuenta el porcentaje de la uva producida en la rioja alavesa que destinan a la

esto está ahí y de eso también se habla en esta y por último

al asesoramiento a facilitar usando las herramientas a su alcance

ese era el elemento fundamental ese era el acuerdo nosotros

básicamente reproducido aquello cambiando el punto número uno sustancialmente

pediremos la votación separada porque votaremos básicamente a favor de la iniciativa salvo en el punto número uno que nos abstendremos por esa discrepancia en relación

como el otro día hablábamos también de la ausencia del consejo regulador

unas funciones importantísimas que cumplir y en la enmienda del otro día no venía nada ninguna referencia al consejo regulador hoy no viene en esta enmienda de transacción en relación con sus funciones o sea que en ese sentido

de la enmienda de transacción cuando dice que nosotros pensamos y creemos que la agencia de información y control

autónomo es adscrito al ministerio de agricultura pesca y alimentación

para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria con la finalidad de controlar los derechos y obligaciones establecidos en dicha ley

instruyendo iniciando el procedimiento sancionador si detecta infracciones como se pide aquí no que las infracciones se puedan detectar y esos controles

que ya lo realiza de oficio el año pasado aproximadamente cincuenta los que realizó la campaña pasada o sea que ahí están

este organismo autónomo adscrito al ministerio de agricultura quien debe de efectuar desaparece de esta enmienda

tiene que ser llamada a participar y precisamente si el control tiene que ser efectivo tiene que ser a través fundamentalmente de la agencia española

de información y control alimentario el punto número dos bien ya hemos dicho que forma parte también de lo que ya se habló en las juntas generales de álava en aquel debate y entendemos que la financiación a las compras de uva de rioja ya se está implementando pero hay que tener en cuenta que muchas bodegas muchas pequeñas medianas bodegas situadas al lado

del otro lado del ebro por muchos motivos por motivos del precio por motivos de

muchas razones y todavía eso es una práctica y es una realidad

en cuenta en cualquier caso valorando lo que es la rioja alavesa y valorando esa implementación

ya se dijo tanto en las juntas generales como ahora y nosotros estaremos de acuerdo y

ahí está el asesoramiento en materia de viticultura es competencia de la diputación

lo realiza de facto o sea que lo que puede ser esta enmienda es un recordatorio

ya se hace de asesorar formar facilitar herramientas en materia

todo eso es competencia de la diputación lo realiza de facto lo que interesa a los viticultores y bodegas es que lo que interesa de verdad en este momento y

es que se dispusiera de una sede del consejo regulador

mi grupo lo ha reclamado reiteradamente el hecho de que el consejo regulador esté presente también para esas funciones de cercanía de asesoramiento y de fomento sería más cómodo y más eficaz para realizar muchos trámites y eso desde luego tiene que ser estudiado por eso mismo también hubiesemos visto bien que también

labores también de asesoramiento porque es un actor muy importante en ese sentido ahí están las cuestiones reiteramos un debate producido en las juntas generales de álava nosotros he explicado las razones votaremos a favor de la enmienda de transacción salvo el primer punto de la no mención de la agencia

no podemos estar plenamente de acuerdo pero en cualquier caso nos abstendremos muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

razonable la iniciativa que presenta bildu y precisamente por eso hemos hecho un trabajo en equipo entre distintos grupos para poder suscribir una enmienda transaccional que por lo que veo el partido popular ciudadanos de alguna forma también está de acuerdo con ella aunque el señor barrio se ha enredado un poquito con

que no desaparece de escena simplemente que en la enmienda

un elemento más de control de inspección que es la dirección de calidad

su capacidad de hacer cosas depende del soporte legal que tenga de lo que la ley le permite

de poder sancionar es más es una iniciativa que salió un gobierno de su partido y que después se ha ido modificando

que en estos momentos está también en fase de modificación porque se le quiere dotar de más herramientas de más instrumentos

de la alimentación hay que darle valor al conjunto de los agentes y muy especialmente

y es que el sector agroalimentario es competitivo es competitivo puede perfectamente moverse por el mercado tiene mercado

y es capaz de llegar no solamente a las necesidades de alimentación de nuestro país sino también

que se hace en los distintos eslabones de esa cadena de valor donde ciertamente quien comercializa

una mayor capacidad de obtener rendimiento incluso en ocasiones se juega y se especula con los productos

y quien produce siempre está en una cierta posición de desventaja porque necesita producir y vender porque no tiene capacidad para porque no tiene capacidad para transformar

muchas veces son productos muy perecederos que necesitan del paso siguiente la transformación y la comercialización que ya está en otras manos

hacer lo que está dentro de nuestras capacidades desde el parlamento vasco y desde el gobierno vasco para ayudar a que

elemento de competitividad que si tiene el sector agroalimentario signifique que tiene una rentabilidad equilibrada

lo que se plantea es proteger en este caso al sector productor de uva proteger el

incluso con una rentabilidad no solamente pagar por el coste de producción sino tener una rentabilidad porque es

y de que pueda haber relevo generacional y de que se puedan sostener

muchos autónomos y muchas pequeñas empresas que se dedican a la producción de la uva queremos también

ayudar a la formación

de este sector al asesoramiento de este sector

para que consiga mejores rendimientos en producción en calidad en economía

medioambientales y queremos fortalecer los sistemas de inspección para que

seguir esos contratos que son ya exigibles por ley y que van a ser más exigibles por ley que los productores tienen derecho a hacer contrato a saber en qué precio se va a pagar y además a saber cuándo se les va a pagar

por debajo de esos costes de producción y que esto efectivamente hay una ley que ya lo ampara y que además en estos momentos se está reforzando como se está haciendo también

su importancia es un respaldo al sector productor en este caso de la uva pero sin duda tiene una mayor extensión

que afecta a los productores de los productos agroalimentarios que son el eslabón más débil de la cadena y que serán los que hay que ayudarles más

y desde la actividad parlamentaria como estamos haciendo en estos momentos muchas gracias eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak molina andrea zurea da hitza

esa frase está sacada de este contrato de la última campaña para elaborar vinos

de origen calificada rioja la cláusula más importante de una compraventa en la que se vende uva sin precio un contrato que fomenta la inestabilidad y la incertidumbre

nosotras y nosotros sabemos hasta el último céntimo que vamos a cobrar y cuándo va a ser ingresado en la cuenta ellos conocen todos los gastos pero no saben lo que van a cobrar no parece lógico verdad en ningún mercado ocurre eso

como que se respete el precio de coste y el trabajo de los productores de uva remunerar al agricultor por su trabajo porque para dignificar una marca

vender por debajo de los costes es insostenible y vender para cubrirlos no tiene sentido por supuesto que no todas las bodegas pagan precios bajos

de hecho hay bodegas que pagan mejor en agradecimiento a la labor de los viticultores sin embargo esto no debería ser una excepción sino una norma y por eso hay que poner en evidencia

porque los viticultores de rioja alavesa trabajan con mimo y ofrecen uvas de mucha calidad

no se puede aceptar que no obtengan apenas beneficios por su labor porque son además quienes mantienen vivos los pueblos son esenciales para mantener la cadena de valor y la comarca y una denominación de origen calificada no puede consentir que esto suceda son muchos los factores que hacen que el viticultor sea siempre

una de ellas el consejo regulador de origen calificada rioja que mira para otro lado y no protege a nuestros viticultores

un sistema basado en el volumen y no en la calidad que es lo que representa a rioja alavesa y a sus vinos una denominación de origen calificada no puede permitirse que haya uvas mal pagadas y por supuesto no puede ser que la rentabilidad sea a costa de crecer crecer y seguir creciendo

la actual ley de la cadena alimentaria establece que cada operador deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción

para hacerla más comprometedora y aunque esos cambios se valoran positivamente consideramos que se quedan cortos porque la ley en muchos casos sigue sin cumplirse y porque no incluye por ejemplo la prohibición de ventas a pérdida en el último eslabón incluso faltan instrumentos para su cumplimiento como es el de la dificultad

me he referido por eso desde el partido nacionalista vasco reclamamos que las actuaciones de control inspección y sanción se hagan desde gobierno vasco ya que actualmente están muy limitadas esas actuaciones porque la agencia de información y control dependiente del ministerio de agricultura y pesca es la encargada de inspeccionar controlar y sancionar

la competencia del control de los contratos es de aica y de las comunidades autónomas

en virtud de dónde estén los operadores implicados en la relación comercial si están en comunidades autónomas diferentes como es el caso de la denominación de origen rioja

y cuando por razón de trazabilidad previsible de la mayor parte del producto es decir

comunidad también es aica la que tiene esa potestad sancionadora

en aquellas cuestiones en las que incluso las partes contratantes son de la propia comunidad autónoma en base a una trazabilidad prevista cómo se valora lo previsible es difícil pensar que los contratos más sustanciosos no vayan a afectar a un ámbito superior de la comunidad autónoma

pero a pesar de las limitaciones nuestra administración con los recursos que tiene a su disposición a los viticultores cuando ha detectado que alguna de las bodegas no ha cumplido debidamente el contrato pactado ha intervenido para dar solución como así lo reconoció en este parlamento la sailburu tapia para que el gobierno vasco siga trabajando en esa dirección consideramos fundamental que cuente con mecanismos fuertes de control e inspección que acaben con el abuso que sufren muchos viticultores desde nuestro grupo también seguiremos trabajando como lo hemos hecho siempre en favor de

y mejorar las condiciones de los viticultores para que tengan precios justos y mantengan así

al igual que seguiremos trabajando en el reconocimiento de la identidad y la calidad que representa a rioja alavesa

donde el kilo de uva se paga entre cinco y siete euros mientras aquí hablamos de céntimos allí hablan de euros los agricultores de otras regiones europeas viven dignamente

si nuestra uva es diferente habrá que pagarla vamos a seguir el ejemplo de lo que funciona porque es garantía de pervivencia y hablo de pagar la calidad y hablo de diferenciación

hay que buscar el equilibrio y dotar de seguridad a los viticultores de la comarca y con ese objetivo

a la que aprovecho para agradecer a bildu

por esta enmienda bueno no quiero repetirme mucho como ya han hecho mis compañeros en el primer punto

que el gobierno vasco cuente con instrumentos fuertes que ayuden a acabar con ese pago de precios bajos no sin perjuicio por supuesto del marco que tiene que llevar a cabo y que se cumpla la ley de cadena alimentaria por lo tanto lo que tratamos con esto como ha dicho el señor prieto es hacer los deberes aquí

segundo punto también instábamos al gobierno a que en las bases reguladoras de las ayudas

aquí por ejemplo en lehiatu ya se contempla

para esas ayudas aunque nos parece lógicamente que se tiene que ir incentivando

ese número y seguir adelante con iniciativas como el basque wine que engloba las referencias de vino que tienen al menos el ochenta y cinco por ciento

y en el tercer punto por supuesto también que se continúe con ese asesoramiento como ya se hace

esa colaboración para que el sector siga vivo y se mantenga

en definitiva consideramos que es un buen acuerdo el próximo sábado día quince será el día del mundo rural y este acuerdo nos parece la mejor manera de celebrarlo y de reivindicar un mundo rural vivo y por eso

vote toda la enmienda en su conjunto porque insisto en que no estamos

no estamos nombrando ni quitándole competencias si quiere otro día discutimos la competencia encantadas

nuestra pero de momento estamos instando al gobierno a que aquí dentro de sus competencias pues pueda aumentar esas revisiones para que sean

y para ir terminando quiero poner en valor el potencial auténtico y singular que tenemos con trabajo conjunto podemos lograr que rioja alavesa sea una región vitivinícola líder a nivel mundial porque tiene todos los componentes para serlo

darles estabilidad evitar los vaivenes del precio de la uva atraer a las mujeres al sector lograr relevo generacional y seguir desarrollando la comarca y en eso insisto se logra desde la responsabilidad y el compromiso de las bodegas los viticultores las instituciones el consejo regulador y la sociedad todo el mundo tiene que estar implicado dice el refrán que las uvas con queso saben a beso y yo me atrevo a decir que las uvas bien pagadas deberían ser sagradas

o la última es que prácticamente casi todo está dicho pero bueno en cualquier caso voy a motivar la razón por la cual vamos a votar favorablemente a la

la invitación al grupo popular ciudadanos a que se sume básicamente porque consideramos que

juntas de álava aquí es importante dar una muestra de unión respecto a una cuestión que creemos que compartimos

yendo a la cuestión de fondo y ya se ha mencionado que

ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria abordó

en la cadena alimentaria y es conocido por ser un tema frecuente en los medios de comunicación y también por ser una cuestión denunciada

colectivos que trabajan la cuestión que

no se cumple y que las medidas de control y de sanción tampoco se aplican en las medidas o en la intensidad debiese hacerse por toda la geografía española se han producido denuncias de los viticultores

por ejemplo la coag denunciaba coacciones a los viticultores para que firmasen

con precios por debajo de costes en septiembre de dos mil veinte también conocíamos que los bajos precios lejos de los costes de producción marcados por el ministerio de agricultura

vendimia y así está reflejado en diferentes medios de comunicación y en denuncias planteadas por parte de diferentes colectivos

en contratos el ministerio de agricultura fijó entre cero coma sesenta y cinco y cero coma sesenta y siete euros el coste de un kilo de uva tinta de acuerdo con la campaña de dos mil diecinueve y de cincuenta y cuatro céntimos para la uva blanca en cambio en muchos contratos

lo que se hacía y ya se ha mencionado era incluir cláusulas a nuestro entender absolutamente ilegales

y lo que fija la ley y añadían una coletilla básicamente en la que obligaban al vendedor a que fijará en el contrato que el coste efectivo de producción de la uva era el que figuraba en el contrato no siendo real

con el paso del tiempo y no ha habido ninguna medida tendente a ponerle fin con la ya vuelvo a repetir intensidad que creemos desde nuestro grupo parlamentario y por tanto en este sentido parece evidente que vigilar la adecuada aplicación de la ley de mejora de la cadena alimentaria

para todos los poderes públicos y también incorporar incentivos en los programas de ayudas dirigidos a las bodegas puede ser también un acicate

del valor en la cadena de producción vitivinícola no olvidemos y

que la consejera de desarrollo económico e infraestructuras del gobierno vasco arantxa tapia incrementó en julio de dos mil veinte el límite de la ayuda de financiación bonificada que pasó de doscientos mil euros hasta un millón quinientos mil euros

una petición que se venía trasladando por parte de diferentes colectivos y que se cumplió parece oportuno y razonable exigir que esas ayudas también sirvan para asegurar la sostenibilidad de toda

creemos que es una medida oportuna lo que se fija en la propuesta de transacción ante también la anunciada liberalización del cultivo del vid que ha introducido la unión europea

cultivadas y esta liberalización podría resultar en una pérdida de cuota de mercado en favor de productores ubicados en la comunidad autónoma

parece razonable proteger al viticultor de la rioja alavesa que puede enfrentarse en el futuro

por culpa de la ampliación del número de hectáreas cultivadas allende

adecuada la propuesta también que se hace en el segundo punto y luego respecto al tercero efectivamente y esto ya se ha hablado en más de una ocasión cuando hemos

esta cuestión efectivamente la agricultura es una actividad fundamental para la conservación del

la fijación de la población en zonas rurales y la conservación de un patrimonio cultural de gran valor es verdad que hubiese sido deseable que en la propuesta transaccionada como la propia original

parte referida a este tercer punto pero en cualquier caso nos parece que abre una oportunidad de plantear modelos de desarrollo sostenible apoyando la actividad viticultura y bodeguera en la rioja alavesa

que esta cuadrilla tiene una de las mayores tasas de paro de euskadi y que además se está produciendo una pérdida de población y de envejecimiento

que complemente la actividad agrícola con actividades formativas la innovación el establecimiento de observatorios tecnológicos y la difusión de las mejores prácticas no solo

para la comarca y en este sentido creemos que la transacción planteada

que se mencionaba y creemos que debiesemos de dar una muestra de apoyo a la misma por parte de todos los grupos parlamentarios aquí representados eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko berriro mahaiburu andrea simplemente por contestar un poquito y
ahondar un poco en algunos de los temas que se han tratado a lo que

creo que le ha contestado el señor prieto y la señora molina y nosotros también pensamos que cada uno en la medida de sus posibilidades y desde los distintos estamentos

lo que le han comentado los demás grupos que sería interesante que apoyara también el primer grupo de todas formas

que el otro día se me quedó también un poco en el tintero gure taldeak bi ekimen aurkeztu ditu joan den astean

está claro que la denominación de origen rioja cuenta con una imagen con una marca y con un reconocido prestigio internacional

con un posicionamiento de mercado tan consolidado y esto es una cuestión indiscutible ahora bien decíamos el otro día y reiteramos hoy que viñedos de álava es una iniciativa un proyecto

porque ven que en sus intereses su modelo de negocio están ninguneados en el consejo regulador y están reivindicando una

no una obligación para las bodegas de la comarca y nos parece que hay que apoyar

exactamente igual que se apoya la opción de seguir en la denominación de origen rioja exactamente igual

y en cualquier caso nos gustaría subrayar también que el descontento con el funcionamiento del consejo regulador de origen rioja no es exclusivo de este lado de la muga que al otro lado como en este la situación también paradójicamente choca mientras que gracias a ayudas europeas se realizan inversiones millónarias y grandes empresas de otras zonas del estado se asientan en la rioja la sangría de bodegas y viticultores de la zona se ha convertido en una constante en los últimos años

y dieciséis por ciento de viticultores menos y nos preguntamos dónde ha estado el consejo regulador

denuncia que las bajas se dan entre sus filas y denuncia que las decisiones del consejo regulador se toman primando la cantidad a la calidad falta de apoyo y leo palabras textuales denuncian que en este sistema únicamente se sobrevive creciendo en hectáreas o en volumen de producción con el control de grandes compañías y multinacionales para las que rioja solo es una parte de su negocio

a quienes apuestan por esa tierra y a quienes invierten su patrimonio en exclusiva

que antes he mencionado el grupo rioja se ha dado prisa en asegurar que sus bodegas han cumplido con la ley de cadena alimentaria y matiza que los costes

recogen las horas trabajadas por las personas viticultoras y la ayuda familiar creemos que es que no podría ser de otra manera y dice también que no se recogen las ayudas que se perciben

con las ayudas de los viticultores lo mismo que sucede con la remolacha y con otras materias primas

creo que queda bastante claro que las reivindicaciones son las mismas a un lado y al otro de la muga entre álava y la rioja y que no es una cuestión de política sino de necesidad de supervivencia y de modelo reiteramos la necesidad de tener en cuenta las reivindicaciones de estos agentes y respetar su capacidad de saber qué es lo mejor para sus negocios

creemos que habiendo voluntad de colaborar empatía y respeto mutuo es posible ir evolucionando sin dejar a nadie atrás

hoy hemos dado un paso más en esta dirección y de nuevo a todos los grupos

cuestiones la primera para nosotros era importante que figurase la agencia la agencia de información y control alimentario que figurase como figuró con normalidad en la iniciativa en la enmienda de transacción

la dirección propia del gobierno vasco también hubiese

deliberadamente apartar a una institución fundamental fundamental en el debate en el que estamos teniendo absolutamente fundamental y por eso pues yo lo echo de menos y no puedo apoyar al completo ese primer punto

mostramos la unión de verdad el apoyo a los pequeños y medianos

viticultores agricultores en relación con sus necesidades y ahora lo tienen que materializar desde luego las instituciones el gobierno vasco la diputación el gobierno de españa desde luego tienen que dar esas ayudas tienen que materializarlas y ese es el elemento fundamental y nosotros desde luego

y por último pues no podía faltar la obsesión no podía faltar la obsesión la obsesión de bildu con el consejo regulador esa labor de acoso en relación con una institución tan importante tan fundamental para el vino de rioja para rioja alavesa

defectos y con sus virtudes pero que es una institución desde luego

apoyada en el que se integran en el que trabajan y el que nosotros

al gobierno vasco una mejor y más estrecha colaboración y desde luego apartar las obsesiones que no nos conducen más que un empobrecimiento de la realidad de rioja alavesa muchas gracias eskerrik asko

porque creía que no lo íbamos a hacer nadie porque creía que había el consenso suficiente pero

ha hecho una especie de rueda de prensa en el segundo turno ya que no había réplica porque no había contradicción entre los argumentos

y no había ningún elemento de controversia y por lo tanto usted ha traído como

en esto recordaré dos frases una que dice

si no es para mejorarlo y la otra recordando a jorge oteiza
no malogres tu carrera de perdedor por un éxito de mierda muchas gracias eskerrik asko

zuen babesa eskertzeko y aprovechando también me gustaría poner en valor el trabajo y el esfuerzo que está llevando a cabo estos días el departamento de osakidetza en los cribados que está desarrollando para la campaña

que lo está haciendo con éxito como ya lo hizo
en la vendimia pasada eskerrik asko eskerrik asko molina andrea

gure taldeari asko kezkatzen gaitu la juventud en euskadi lleva viviendo dos crisis gigantes en una época fundamental en sus vidas la crisis del dos mil ocho

modelo que por otra parte sigue ahora mismo en marcha y aún más caduco que entonces

precariedad y sobre todo cortar las expectativas de mejora de la calidad de vida para la juventud especialmente para la juventud trabajadora en euskadi

hay que salir de otra forma y de forma urgente hay que tejer hay que seguir tejiendo y tejer aún más una malla de seguridad que dé condiciones dignas para que la gente

arrakala handia erakusten dizkigute y la situación que describen

es bastante preocupante un cuarenta por ciento de las personas jóvenes que trabajan en euskadi tienen miedo a perder su puesto de trabajo un cincuenta y cuatro por ciento piensa que jamás va a trabajar con algo relacionado con sus estudios o que el setenta por ciento de los contratos

en las personas menores de treinta y cinco años son temporales frente al treinta y uno por ciento de la población en general

de los datos y ya lo hablamos hace unas semanas la edad ideal para emanciparse en euskadi sería

la media europea actual está en veintiséis y en euskadi

en los treinta y además si analizamos los datos

prezio horiek eta hau ez da bideragarria hau ez da bidezkoa no es viable ni es lo que hay ni es lo que tiene que haber hay que cambiar esta realidad

baita ere etxebizitza politika la formación el empleo por ejemplo el reconocimiento de derechos por ejemplo para las personas falsas autónomas

trabajadoras que son garantizar derechos sociales y política de vivienda todo esto tiene que ir de la mano funtsezkoa da etxebizitza politika publikoa indartzea

el decreto del derecho subjetivo aumentar también las personas que se pueden acoger al mismo porque

demasiado limitado a unas rentas muy limitadas la movilización de la vivienda vacía

para el alquiler tal y como mandatan los planes aprobados en este parlamento

hace unas semanas tampoco en un debate de una proposición no de ley pero esperemos que al menos este dos mil veintiuno acabe o el dos mil veintidós empiece

es muy muy muy urgente y también por supuesto mejorar el programa

erregulazioa beharrezkoa dela azpimarratzen por tanto como siempre hablamos de una amalgama de políticas para garantizar la emancipación de la juventud

seguramente estamos trabajando los distintos grupos para mejorar un proyecto de ley de juventud que nos parece totalmente insuficiente y también por lo menos por nuestra parte hablaremos de vivienda eta gaztelaguni dagokionez

esto supone el uno coma uno por ciento que solo el uno coma uno por ciento de los jóvenes disfruta o tiene acceso mejor dicho al programa gaztelagun el margen de mejora por tanto es amplísimo cincuenta y seis

protegida o que el grado de cumplimiento del programa en el segundo plan no llega al cuarenta por ciento por tanto podemos decir que necesita mejorar jakin badakigu orduan hori guztia ez dela

hobetzea decíamos y hemos dicho en los últimos tiempos que hay que revisar el programa

la propuesta de transacción la transacción mejor dicho que hemos alcanzado entre los grupos nacionalistas socialistas vascos y elkarrekin podemos izquierda unida que hay que flexibilizar los requisitos y adaptar tanto la prestación como las referencias al alquiler a la realidad del mercado inmobiliario en euskadi y aquí pues bueno

oficiales es verdad que ahí tenemos una diferencia porque hay dos índices ahora mismo en vigor

y la ofin hay demasiada diferencia entre esos dos

índices pensamos que se tiene que ajustar lo más posible a la realidad que tenemos ahora mismo en el mercado inmobiliario

las diferentes realidades que sufren

joven también en las franjas de edad porque estamos hablando del programa gaztelagun de dieciocho a treinta y cinco años

hay mucha diferencia entre las realidades de unos bloques de edad a otros egia da ez dugula lortu txertatzea zuzenean

horretan nos parece fundamental en ese sentido haber conseguido el compromiso de que ninguna solicitud se quede sin atender porque se agote el presupuesto es verdad que no había pasado en ningún momento pero que si el programa pueda tener un recorrido

en este punto agradecer a los dos grupos que sustentan al gobierno por su disposición al diálogo y a llegar a un acuerdo en este punto concreto también exactamente no sé la posición de voto de euskal herria bildu pero imagino que

de los puntos y si no también les animo a ello porque pensamos desde elkarrekin podemos izquierda unida gaztelagun tiene que mejorar para que sea una herramienta más útil para ayudar a garantizar

vasca y para ello creemos que hemos conseguido un buen acuerdo para flexibilizar los requisitos

en el corto plazo acabar con el límite de los tres años de duración del programa para intentar además que nadie que lo necesite se quede fuera de este programa

aurrera doa y ahora le toca cumplir al gobierno eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

funciona para su propósito principal que es la emancipación de nuestros jóvenes pero no voy a entrar en lo que ustedes piden que es

cuánto tiempo se es joven cuánto tiempo ya no se es joven la unesco dice que hasta las veinticuatro

ese plazo porque entendemos que los jóvenes de euskadi no se emancipan y también ustedes piden la adaptación de los criterios de acceso a gaztelagun para que siga siendo un programa acorde a las necesidades de las jóvenes con respecto al mercado inmobiliario pues cierto el mercado inmobiliario tiene un problema llevamos varios plenos

pero mire lo que yo quería de joven era tener un trabajo y un trabajo acorde a mis cualificaciones y un trabajo bien pagado ojo

del boom inmobiliario de la burbuja inmobiliaria y pagábamos una barbaridad por un alquiler de un pisito con una habitación ojo en la provincia eh cuarto sin ascensor y nada de vivir en el centro de san sebastián por eso para que los jóvenes se emancipen y se independicen lo que tenemos que hacer es propiciar un caldo de cultivo para que vengan muchas empresas para que nosotros tengamos la libertad de escoger un empleo

y sentir que años de estudio y formación sirvan para trabajar en lo que queremos con los sueldos que nos merecemos

y digo estabilidad necesaria porque se nos olvida que hace poco

tiene un treinta por ciento de interinidad y sin embargo el sector público anda rondando el veintidós por ciento

que tiene la juventud vasca y los ciudadanos vascos es que no ha habido en los años que llevamos de democracia una apuesta real y fuerte por la construcción de vivienda de alquiler social

a las pruebas me remito nosotros tenemos aquí en vitoria en la calle mar báltico un edificio entero

sin nadie viviendo en él es un edificio entero que gestiona alokabide pero no sabemos por qué ya me lo contestarán porque ya le

señor consejero lo que hace gaztelagun es que quienes no consigan un trabajo y quienes no consiguen un trabajo que les ayude a pagar los alquileres del mercado libre

estamos de acuerdo pero no se trata de cronificar su situación sino para relanzar su posibilidad de crear un proyecto de vida que les

creemos necesario modificar la normativa que regula las ayudas sociales en euskadi y en especial presentar a la mayor brevedad posible en esta cámara el proyecto de modificación de la ley dieciocho barra dos mil ocho

y la inclusión social así como poner en marcha el resto de las medidas que sean necesarias para subsanar las deficiencias existentes en el sistema de protección social en euskadi porque existe un problema y es que no se protege a todo el mundo de la misma manera porque no puede acceder todo el mundo esas ayudas sociales de una manera justa lo hemos en sede parlamentaria muchísimas veces y del mismo modo instamos al gobierno a realizar un plan de reforma de lanbide para que corrija las disfunciones que actualmente presenta para conseguir la empleabilidad de las personas desocupadas y mientras eso se materializa está muy bien que tengamos programas como gaztelagun pero lo ideal de una subvención es la que se crea

de la vida a la persona demandante y que después

una situación a la cabeza cuando yo fui madre por primera vez mi madre me dijo nunca te olvides de que tu hija te agradecerá siempre será que le des alas

para que pueda volar y si alguna vez cae cúrala

trece años es sabia mi madre pero yo me aplico esto en este momento

a la vida de los jóvenes y digo nosotros en un momento puntual tenemos que ayudarles pero no para siempre entonces cuando ustedes hablan

es de oca a oca y tiro porque me toca eso es lo que ustedes están pidiendo y los jóvenes

quieren que haya suficientes viviendas de alquiler social en el mercado para que ellos puedan acceder a ellas con un trabajo estable

impulsar la economía para que las empresas vengan aquí generen trabajo y de impulsar la construcción de viviendas de alquiler social es que sabemos que hay un problema pero tenemos

que la subvención no es la solución sino simplemente es impulsar en un momento dado para que echen el vuelo y para que consigan

para que como dije la semana pasada para que demos la vuelta a la pirámide poblacional pero es que

en cómo generar una estabilidad laboral para nuestros jóvenes y una vivienda asequible

no vamos a llegar a ningún sitio gracias eskerrik asko larrea andrea

creo que hoy nos van a tener más manía de la que nos tienen normalmente desde este gobierno hemen gara

zuek gaztelagun existitzen dela esaten diozue argudio horrekin jotzen duzue beti parece que estamos jugando al mus y vosotras jugáis siempre a la pequeña ya sabemos que

así estamos a la cola en europa también treinta años de media para la emancipación juvenil

os pedirá cuentas desde ya pero también en el futuro porque ya vale ya no podemos rendirnos

es que horrek ez dauka inolako zentzurik tenéis una manía de creeros vuestras propias mentiras que es que

lo dicen absolutamente todos los días los periódicos la tele twitter y todos

una gracia a mí me hace la precariedad laboral y que los jóvenes no se puedan emancipar muy bien así maravilloso

acaban de denegarme una casa de protección oficial en bilbo porque con mi sueldo de periodista no llegó al mínimo de ingresos que piden con veintisiete años y nueve en lo que

lo que me queda es seguir así o vivir en pareja

guztioi este programa nació en dos mil diecinueve con la intención de apoyar la emancipación juvenil a través de prestaciones económicas para el pago del alquiler

una propuesta desarrollada a instancias de ningún grupo social o político sino una

vivienda los socialistas vascos entendimos que buena parte de la juventud quedaba en muchas ocasiones fuera del sistema social de alquiler por el hecho de tener trabajo

o carecer de cargas familiares remediar esa situación a todas luces injusta ayudándoles a emprender un proyecto de vida autónomo con unas prestaciones específicas durante tres años consecutivos fue precisamente el origen del programa gaztelagun en apenas dos años de vida ha ayudado

que además cuentan con otras herramientas para acceder a una vivienda

y como consecuencia de ello ha ajustado sus requisitos en su primer año de vida mejorando sustancialmente sus resultados en una coyuntura especialmente difícil las mejoras

durante el dos mil veinte una tendencia que sigue al alza hoy en día por otra parte en breve el gobierno de coalición pse pnv va a aprobar una orden de medidas financieras de aplicación para este año dos mil veintiuno

va a incrementar las rentas de las viviendas en todos sus tramos alcanzando los setecientos sesenta y cinco euros en las tres capitales bilbao san sebastián y vitoria gasteiz los setecientos cincuenta en las áreas metropolitanas de bilbao y donostia san sebastián

y los seiscientos setenta y cinco euros en el resto de municipios el informe juventud emancipación y necesidad de vivienda en euskadi dos mil diecinueve señala que la mayoría de los jóvenes que viven de alquiler pagan rentas que oscilan entre los cuatrocientos cincuenta y uno euros y los setecientos cincuenta

que se sitúa en los seiscientos quince euros al mes lo comento aquí porque ya son varias las iniciativas que han venido a esta cámara de diverso tipo que vienen insistiendo en las rentas máximas de las viviendas permitidas en gaztelagun otra gran línea de actividad

de gobierno es la construcción de alojamientos dotacionales una fórmula especialmente pensada

por sus características puesto que se trata de pisos diseñados para unidades convivenciales pequeñas y por su carácter rotatorio ya que permite un máximo de cinco años el propósito es que los jóvenes inicien allí

en este tiempo una vivienda más definitiva para vivir ya sea en propiedad o en alquiler de forma que el apartamento que han dejado libre puedan ocuparlo otras personas en euskadi contamos ya con

de ejecución o proyecto pero para poder seguir avanzando en esta línea de trabajo necesitamos la implicación de los ayuntamientos y su colaboración mediante la cesión de suelo municipal y la tercera de las medidas que se ha desarrollado desde el departamento de vivienda

se trata del establecimiento de cupos en el acceso a las viviendas del parque público de alquiler desde dos mil diecinueve los y las jóvenes tienen reservado un cupo preferente

adjudicaciones del parque de alquiler del gobierno vasco estos cupos se determinan en la orden de inicio de los procesos de adjudicación teniendo en cuenta

de solicitantes de viviendas del municipio o área funcional en el que se ubica la promoción para que sean efectivas las políticas de vivienda tienen que ser integrales coherentes armónicas y consistentes y aplicarse

así lo hicieron los que ahora son nuestra referencia y llevan en ello ya más de un siglo

sobre la oferta y la demanda de vivienda y conjugar medidas de promoción y estímulo con otras regulatorias y en eso está el gobierno de coalición a través de la nueva edificación y de la captación de vivienda vacía en euskadi se dispone ya de un parque público de casi ya veinte mil viviendas de las cuales quince mil son gestionadas por el propio gobierno vasco

incrementarlo dado que se ha marcado como próximo hito de paso duplicar esta actual oferta pública en alquiler asequible en los próximos quince años para finales de dos mil veintiuno se quieren alcanzar las siete mil doscientos viviendas captadas a través

ayudará sin duda la entrada en vigor del decreto de viviendas deshabitadas previsto para mediados de este año

llegando incluso a medidas como el alquiler forzoso o la expropiación temporal de uso y en última instancia la expropiación de las viviendas que no cumplan con su función social con carácter previo a cualquier acción punitiva se mantendrá y se potenciará la oferta pública

el interés general además ya se dispone de un sistema de prestaciones económicas de vivienda para el pago del alquiler de las que se benefician todos los meses más de treinta mil familias en euskadi se quiere además

que esas prestaciones al alquiler se actualicen mediante su incremento para el año dos mil veintidós el compromiso de los socialistas vascos es elevar

que hasta ahora ha sido un piloto temporal de tres años cuya vigencia vence en dos mil veintiuno

será una línea subvencional permanente asociada y vinculada coherentemente al conjunto de prestaciones de alquiler

se ha propuesto una reforma fiscal que plantea un sistema coherente de incentivos y desincentivos fiscales

para las rentas de alquiler de tal manera que se incentiven los rendimientos inmobiliarios que se sitúen por debajo de las rentas fijadas en los índices de referencia y se penalicen mediante la supresión de dichos incentivos sobre los rendimientos netos descontados gastos

asimismo intensificar las deducciones para diversos colectivos como el de las personas jóvenes esa reforma fiscal ya toca en dos mil veintiuno y debe generar efectos a partir de dos mil veintidós por tanto políticas dirigidas precisamente a que los jóvenes puedan tener una oportunidad de manera integral con programas asentados ya en las políticas públicas dirigidas
por el departamento de vivienda para que nuestros jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida aquí en euskadi eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna

no la definimos solo como llegar a acuerdos también

no llegar a acuerdos y confrontar cuando toca pero confrontar con algo que tenga algo que ver con lo que estamos hablando nosotros y nosotras con esta iniciativa no pretendíamos y lo voy a decir luego vender

ni siquiera con gaztelagun se van a solucionar todos los problemas de las personas jóvenes que viven en euskadi porque sería estar diciendo la mentira de un tamaño bastante estratosférico pero

esta herramienta que existe igual quizás desde nuestro grupo parlamentario si estuviéramos en el gobierno lo habríamos diseñado de otra forma

quizás no pero estamos en este momento que pensamos que tiene

no solo aquí en euskadi el conjunto del estado en europa no se va a solucionar solo con un programa de ayudas al alquiler de viviendas

como acabar con la reforma laboral de dos mil doce que precarizó la vida de millónes de personas en el estado español y especialmente de la juventud acabar con ese horizonte de que las empresas puedan hacer contratos temporales porque les dé la gana o porque supuestamente le sale más barato que ni eso

precisamente tener a la gente explotada obligada a

eso se está haciendo pero estamos hablando de una iniciativa en concreto

en los últimos en las últimas semanas hemos llegado a dos acuerdos en materia de vivienda

con el gobierno esta vez solo con uno de ellos y

toca cumplir al gobierno los acuerdos que hemos tomado en este parlamento

o muy difícil llegar a acuerdos en materia de vivienda también lo fue en la pasada legislatura pero es un texto la ley de dos mil quince que nos puede

de la movilización de la vivienda vacía llevamos muchas veces hablando de ese decreto está en el calendario lo sabemos pero lo vamos a analizar también con detalle para que cumpla el objetivo

y que no se vaya reduciendo ese objetivo de movilización de vivienda vacía como se ha ido viendo en las estadísticas del propio gobierno y que esas viviendas miles las que sean las que toquen o sea si son trece mil o si son treinta y cinco mil las que toquen se movilicen de una manera rápida y efectiva para que la gente

y lo vuelvo a decir sin renunciar a una cosa que nos parece fundamental junto al resto de la política de vivienda que tenemos en euskadi a una cosa que es fundamental en este momento

de crisis del sistema económico en el que vivimos y de tensión del mercado inmobiliario especialmente en las tres capitales y en las áreas urbanas como es la limitación de los precios del alquiler

para que más personas puedan acceder a ese mercado privado y además pensamos que es bueno incluso para los propietarios de las viviendas por tanto vuelvo a decir valoró y valoramos mucho este acuerdo estaremos encima también de que se cumpla que a partir de dos mil veintidós de ese primer trimestre porque

vamos a ver si esta vez se cumple se adapte este programa para que llegue a más gente para que se aumente el presupuesto que no se agote como hemos dicho hasta ahora y que ninguna ayuda se quede

sin ser gestionada y sobre todo nos parece importante una cosa que se ha dicho aquí que se elimine ese tope de tres años y que se

necesiten más adelante pero en ese tránsito hacia o ese posible tránsito hacia la prestación de vivienda

y los colectivos vulnerables en este caso a la juventud por tanto volvemos a decir valorar el acuerdo de mejorar gaztelagun de eliminar los topes de aumentar el presupuesto

gente porque sin ser la solución para el conjunto de los problemas de la juventud pensamos que va a ser una herramienta que puede ayudar a un colectivo

en mi postura cuando ha dicho la representante de bildu que

en el que decía que una persona no llegaba al mínimo de ingresos para recibir un piso de alokabide y cuando la señora del pnv le contesta puede que

lo que me viene a reafirmar es que tenemos un problema estructural

en euskadi por lo tanto lo que no puede ser es que a alguien en alokabide se le rechace el acceso porque no llegue a los mínimos es que claro sí sí que puede hacer todos los gestos que quiera pero es que clama al cielo todas las personas que nos estén escuchando ahora mismo entenderán que alokabide lo que tiene que hacer es

que le digan que el requisito mínimo no lo cumple que es el de los ingresos cuando ya está trabajando hombre pues igual hay que modificar ese tipo

modificar tenemos que empezar ya a modificar las leyes que no están ayudando a nuestros jóvenes a emanciparse

que hasta que no se haga una reforma estructural de todo el sistema de ayudas sociales en euskadi

y el martes leí en un consejo de gobierno

dotado de nueve coma cinco millónes el programa de gaztelagun bienvenidos sean claro es que hay muchos jóvenes que lo necesitan pero desde mi punto de vista tenemos
que afrontar una reforma integral gracias eskerrik asko larrea andrea

martínez la disposición a llegar a acuerdos creo que ha sido fácil principalmente porque

su propuesta como nuestra enmienda estaban muy cerca y ciertamente ha sido

a un acuerdo yo coincido con usted en que evidentemente la solución

única y exclusivamente en políticas como las de gaztelagun sino que más allá de eso evidentemente todo tiene que girar en torno a políticas

que abarquen a más de un departamento y es lo que está haciendo hay una estrategia fijada por este gobierno que precisamente se basa en políticas transversales que hacen posible que la emancipación juvenil y la mejora no slo de un acceso a la vivienda sino más allá de eso las condiciones laborales las oportunidades

vaya en constante mejora desde luego a mí sí me gustaría preguntarle

bildu porque habla mucho de políticas de vivienda innovadoras y lo repite una y otra vez

creo que no ha habido ninguna a mí sí me gustaría que vinieran aquí que presentaran

de las iniciativas que consideraran oportunas cuáles son esas políticas de vivienda

me habla de manera genérica cuando hasta la fecha ha salido a hablar

podamos conseguir mejorar los instrumentos las herramientas las políticas que tiene este gobierno

consideramos que se debe mejorar y que se debe seguir

única y exclusivamente ha tratado el tema de los tramos de edad que precisamente

de insistir tanto en la cuestión relativa a los tramos de edad en fin yo le sugeriría o le invito desde luego a que aproveche sus oportunidades y desde luego

un debate sobre lo concreto y no sobre lo genérico más allá discursos que bajo mi punto de vista poco aportan quizá parafraseando a pío baroja le podría decir que sus discursos son algo parecido al café

que altera pero que desde luego no alimenta eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna

zuzenketa cuando vi su enmienda señora larrea la verdad es que me sorprendió pensé que incluso se había equivocado de pnl

no tenía nada que ver con la propuesta que hoy estamos discutiendo estábamos hablando de un programa concreto elkarrekin podemos proponía una proposición de ley sobre el programa gaztelagun y usted estaba hablando de la revisión de la política de ayudas

hoy ha insistido en el tema no sé yo creo que también tenía que haber traído creo yo

que es parte de las políticas de vivienda que desarrolla este gobierno y que desde luego está dando respuesta a un colectivo de jóvenes que como bien ha dicho la señora de eh bildu y usted también lo ha comentado en su réplica

a personas que por sus ingresos no entran en el colectivo de beneficiarios de las viviendas de alquiler social que gestiona alokabide pero que

máximos no llegan tampoco en condiciones para pagar las rentas del mercado libre y a esas personas a esos jóvenes

a muchos de ellos yo creo que viendo que es un programa válido

propuestas para mejorar lo que es desde luego humildemente lo que hemos pretendido hacer los demás besterik ez eskerrik asko